gracias señora presidenta durante

en relación a la situación y al escenario en el que nos encontraremos tras el próximo nueve de mayo

además de hablar de lo que no depende de nosotros sí podemos hacer cosas para garantizar la mayor seguridad jurídica en lo que quede de pandemia con estado de alarma

y esa es la razón por la que los socialistas hemos propuesto junto al partido nacionalista vasco esta proposición de ley de gestión de la pandemia

dispongan de mecanismos legales para poder actuar siendo de aplicación tanto si hay un estado de alarma como si este decae pero si se mantiene una situación de emergencia sanitaria el gobierno vasco ha venido actuando en base a sus competencias estatutarias y a las de las instituciones vascas en materia sanitaria en protección civil en asistencia social

amparado en la ley de salud pública en la ley general de sanidad en la ley de gestión de emergencias los socialistas creemos que debemos sacar el máximo partido al autogobierno eso es lo que hacemos con esta proposición de ley y lo que podremos seguir haciendo con el resto de medidas y en su caso modificaciones que nos permita abordar nuestro ordenamiento jurídico

y poniéndolas en este caso también al servicio de la lucha contra la pandemia en relación a esta proposición de ley nuestra intención ha sido circunscribir el alcance de la norma a nuestro ámbito competencial

hemos tratado de huir de cuestiones absolutamente controvertidas y que exceden ese ámbito competencial tal y como ha podido verse al analizar la ley propuesta por el gobierno de la xunta de galicia que abre la puerta a decretar la obligatoriedad de la vacunación cosa que nosotros no hacemos como saben es la ley general de sanidad del año ochenta y seis la que constituye la primera norma ordinaria que habilita al parlamento vasco

de asuntos porque permite que en el ejercicio del desarrollo legislativo y su ejecución sea este legislador autonómico el que atienda a situaciones con un riesgo grave o inminente para la salud de las personas nuestra intención no ha sido la de hacer una ley general que sea

epidémica que pueda venir en el futuro por un simple principio de realidad las particularidades de cada pandemia la forma de transmisión la virulencia el grado de mortalidad hacen que sea muy inocente pensar que las soluciones que sirven para luchar contra este virus pudieran servir también para responder a otro tipo de crisis sanitarias por eso

las disposiciones generales la regulación de la situación de emergencia sanitaria la ordenación de las organizaciones y sistemas públicos de protección el sistema integral de información de salud para la gestión de emergencia sanitaria

y un régimen sancionador que contribuirá a reforzar también la seguridad jurídica y la eficacia

así como de la evolución experimentada y como no podía ser de otra manera es una ley garantista que expresamente recoge el sometimiento a la jurisdicción contencioso administrativa respecto a la autorización o ratificación judicial de las medidas que se adopten conforme a lo previsto por esta ley o en otras leyes en materia de salud

cuando las mismas conlleven una potencial acepción a derechos fundamentales la solicitud de tramitación de urgencia que no ha contado con ningún voto en contra

responde a la premura en responder a la contención de esta pandemia con el objetivo de que pueda quedar aprobado antes de que finalice el actual periodo de sesiones desde que se anunció la posibilidad de acudir a una norma de este tipo se han dado reuniones con los grupos de la cámara con el objetivo de crear un ambiente propicio al entendimiento

y lograr un amplio respaldo los dos grupos firmantes de esta iniciativa estamos abiertos a las mejoras para entre todos dar respuestas seguras

y ágiles en momentos que son extremadamente delicados algo que será posible si todos actuamos con responsabilidad y actitud constructiva por nuestra parte será así con la toma en consideración de esta proposición de ley para la que pido su voto a favor pondremos en marcha una ley que responde a este momento excepcional

y que refuerza los mecanismos para garantizar la salud y luchar contra el virus y en esa lucha debemos estar todos

pero independientemente de mis sueños y mis deseos también sé y mi grupo lo sabe que esta ley en estos momentos se nos presenta como imprescindible y urgente aunque no sea la ideal y

es probable al menos si nos atenemos a las declaraciones del presidente del gobierno español

e independientemente de que nos parezca una decisión precipitada

requerirá de nuevos armazones jurídicos que nos permitan continuar luchando contra la pandemia el covid diecinueve apareció por sorpresa en nuestras vidas y en nuestra sociedad y no parece que se vaya a ir de la misma manera sino que su desaparición

enfermando a las y los ciudadanos provocando ocupaciones en camas de hospitales y uci que podrían

a pesar del desconcierto que se provocó en los primeros momentos las instituciones reaccionaron con los medios de que disponían en aquel momento pero reaccionaron lo que no evitó que enfermara una cantidad importante de ciudadanos

si bien hubo un frente sanitario preparado que se preocupó intensamente de salvar vidas

los cuales desde el primer momento supimos que se producían por el contacto social de ahí que el lehendakari apoyándose en legislación general sanitaria en legislación sanitaria propia y en ley de emergencias proclamara la emergencia sanitaria en euskadi cerrando los servicios educativos y restringiendo todo tipo de eventos y reuniones colectivas poco después

vino a establecer un estado de confinamiento radical que duró

y que vino a sustituir a todo otro tipo de normativa aunque intentando establecer un modelo de cogobernanza

a la grave situación que veníamos pasando a partir de ahí y una vez pasado un verano más o menos tranquilo los nuevos repuntes de la pandemia volvieron a surgir y nos encontramos con un sistema legislativo que se reveló escaso para lo que se pretendía desde los poderes públicos

recuerdo que fue el lehendakari el primero que lo demandó en tanto había comprobado que las medidas que debía tomar para frenar el ascenso de contagios requerían de un soporte jurídico superior

en una sociedad utópica donde todos fuéramos querubines no sería necesario normar para dificultar esas relaciones sociales

pero somos animales sociales y a veces razonablemente contrarios a las normas lo que lleva a los poderes públicos a tener que normar

y a tener que vigilar que esas normas se cumplan y ante esta pandemia y con el único objetivo de que no se extienda

la expansión de la enfermedad normas soportadas en informes técnicos que conocen la evolución de la pandemia y que en general supone limitar la libertad de la ciudadanía y eso requiere argumentos sólidos para poder hacerlo sin que abran una panoplia de recursos y contrarecursos

en el poder judicial porque la justicia está para establecer lo que es justo o injusto en función de las leyes que aprueban los poderes legislativos y que aplican los ejecutivos pero no parece lo óptimo que se conviertan en órganos que permanentemente diriman

base de la que parece que tampoco dispongan mucho los jueces

a que ante decisiones similares de diversos poderes ejecutivos el poder judicial ha tomado decisiones dispares

en definitiva y con todo mi respeto a su labor y misión debemos tener normas jurídicas que permitan tomar decisiones sin que estas sean objeto de debate jurídico posterior

evidentemente siempre que sean equilibradas para el objetivo perseguido

y este proyecto de ley que presentamos el grupo socialista y el grupo nacionalista pretende ser ese armazón que permita al gobierno tomar decisiones en las diferentes situaciones posibles

defender por encima de todo la salvaguarda de la salud de todas y todos con un método de equilibrada limitación de libertades coyuntural temporal

de los más desprotegidos por diversas circunstancias como pueden ser la edad o la falta de recursos este proyecto de ley no se lo voy a desgranar porque todos lo conocen al menos lo tienen en sus manos desde hace suficientes como para haber profundizado en él

con otra específica para esta pandemia con el máximo rango jurídico y expresamente hecha para el covid diecinueve con la experiencia que tienen las instituciones de llevar un año lidiando con esta pandemia por eso se incluyen con concreción los diferentes estadios por los que pueda pasar el grado de infección del covid

así como las diferentes medidas que se puedan tomar para reducir la infectabilidad del virus porque este proyecto de ley

específica pero a la vez derivada de una experiencia dilatada en la lucha contra esta específica pandemia este proyecto es crear algo jurídicamente sólido

sobre suelo jurídico propio la mejor manera de preservar la salud de todos aunque tenga que hacerse limitando coyuntural y temporalmente algunas libertades para lo que por cierto en ciertos casos la propia ley establece la salvaguarda de la consulta a los jueces en cualquier caso

el debate sobre sus contenidos y hasta dónde queremos que pueda llegar empezará mañana y ahí nos gustaría contar con la voluntad de todos los vascos y que incluso

de una ley de sanidad del estado se pare también a analizar una ley vasca hecha con nuestros recursos competenciales y jurídicos que por escasos que puedan parecer

de la lucha contra una pandemia que nos ralentiza y por momentos nos paraliza sé que a unos gustarán unas normas y unas limitaciones a otros otras diferentes incluso a otros entre los que me incluyo

para legislar sin depender de otras normas pero estamos en lo que estamos y sugiero que podamos ponernos realistamente de acuerdo en un catálogo

y sobre todo démosle a esas limitaciones posibles un paraguas jurídico que permita su aplicación sin temor a que puedan ser paralizadas o neutralizadas cuando la emergencia sanitaria esté vigente

este proyecto de ley se presenta con vocación de consenso de pacto de intento de acabar con unos debates que a nada nos llevan y que desconciertan a una ciudadanía

cuando se trata de luchar contra un virus que pretende acabar con la salud de todas y todos nosotros sin distinción de colores si la pandemia nos iguala

pandemiak berdintzen bagaitu berdindu gaitezen pandemiaren aurka a unos nos gustarán unas medidas a otros

es que todos queremos acabar con esta pandemia cuanto antes que todos queremos que nosotros y para nosotros y toda la sociedad recuperar una normalidad perdida unas libertades arrumbadas por momentos y una seguridad en que nuestra salud no será atacada

eta guztion artean pandemia horren aurka borrokatzeko tresnak eskainiko ditugula y aunque tampoco sea la ley que todo lo solucione

termino como he empezado trabajemos rápido para elaborar esta ley como un instrumento más contra la pandemia para que ojalá

buenos días señorías un gobierno con mayoría absoluta y que impone su rodillo sin pudor recurre a argucias para crear

pese a haber tenido tiempo más que de sobra pese a conocer desde hace muchos meses sus limitaciones para imponer determinadas restricciones recurre a la fórmula de la proposición de ley para acortar plazos y lo que es aún peor para evitar informes que podrían ser contrarios a sus pretensiones

ese despropósito que afortunadamente europa ha parado había tiempo de sobra para tramitar un proyecto de ley

se opta por la proposición de ley y se preguntarán por qué lo hacen

restricciones e imposiciones que además están demostrándose absolutamente inútiles según las explicaciones de este gobierno el aumento de los contagios es debido a que existen los días y las semanas festivas a que bares y restaurantes están abiertos

y que la gente no les cuenta dónde se contagia y haciendo qué

ley para empezar es consecuencia de una mentira una más de un psoe liderado por alguien que no conoce el significado de la palabra verdad que hace poco menos de un año anunció la tramitación de una ley nacional que aportaría esa seguridad jurídica a las comunidades autónomas y al propio gobierno de españa

para mantener el estado de excepción encubierto que imponen con la excusa del estado de alarma anuncio propagandístico para en un año no hacer absolutamente

de la ley la explicación es conocida que jueces del tribunal superior de justicia del país vasco no uno sino tres afearon a principios de año

al decretar el cierre de bares y restaurantes sin informe alguno que avalara tal decisión

inequívoca de dicha actividad con la aceleración de los contagios no es que el gobierno vasco carezca de respaldo jurídico es que pretende hacer sin rendir cuentas a nadie sin justificar nada evitando cualquier tipo de control por cierto seguimos esperando los informes en los que el gobierno vasco el cierre de la hostelería me detengo solo un minuto en el artículo catorce de esta proposición de ley en el punto tres ese que pretende hacer de la vacunación

el gobierno pretende impedirle el desempeño de tareas o la imposición de restricciones personales casi nada

con esta ley señores del gobierno vulneran la reserva de la ley orgánica tres barra mil novecientos ochenta y seis conforme al artículo ochenta y uno de la constitución vulneran el artículo ciento dieciséis de la constitución y de la ley orgánica cuatro barra mil novecientos ochenta y uno del uno de junio

y particularmente vulneran las competencias del artículo catorce punto tres cuando prevé la exigencia de vacunación en contra del acuerdo sobre la estrategia de vacunación aprobado por el consejo interterritorial del sistema nacional de salud el veintiocho de enero del dos mil veintiuno esto aquí y en cualquier sitio se llama autoritarismo el de un gobierno y sus partidos que han demostrado una fatal incapacidad para gestionar la crisis sanitaria y a un solo dato me remito quinientos positivos por cada cien mil habitantes frente a por ejemplo los menos de cincuenta de la comunidad valenciana sin duda un aval para el gabinete de urkullu como gestor incuestionable de esta pandemia ustedes lo saben pero por si acaso se lo recuerdo vox defiende aquí y en el congreso de los diputados un plan

de una crisis que va más allá de las fronteras nacionales muchísimo más allá de las ficticias fronteras de las comunidades autónomas esas que ahora permanecen cerradas

vox reivindica la devolución de competencias en materia sanitaria al gobierno de la nación para una gestión nacional de la pandemia

habrá que ver en qué queda todo esto pero el recurso ante el tribunal constitucional parece que será necesario para impedir que este gobierno se arrogue competencias que no le corresponden para evitar que nos impongan lo que no pueden imponernos para impedir que hagan a su antojo sin vigilancia sin control y sin rendir cuentas en definitiva

señorías miembros del gobierno miembros todos de este parlamento se nos ha presentado en este parlamento

que viene de los dos grupos del gobierno una proposición de ley relativa y así dice su título a las medidas para la gestión de la pandemia y se nos ha presentado como digo por parte

como un proyecto de ley y yo creo que aquí parafraseando y citando a un compañero parlamentario creo que es necesario

partiendo del contexto no solo un contexto social sino también un contexto jurídico y parlamentario

yo no creo que ninguno de los parlamentarios miembros del gobierno personas que estemos en este momento en esta sala puede estar en contra de cualquier tipo

la lucha contra la pandemia hoy día es no solamente una necesidad vital sino que es algo que nos une y es una pena porque yo creo que quiere el gobierno el gobierno vasco y el gobierno de la nación sobre todo

sobre todo de plantear unas medidas que fueran aceptables y razonables por parte de todos en primer lugar el contexto cuál es el contexto mire todos ustedes saben señorías en el ámbito parlamentario hay tres vías para presentar

una propuesta de ley dejando al margen la iniciativa legislativa hay otras dos vías una es el proyecto de ley que consiste en que el gobierno como desarrollo

plantea al parlamento pues un proyecto de ley un proyecto de ley además que tiene que ir

de una serie de informes de una serie de garantías jurídicas y de una serie de documentación que es la que luego el parlamento va a tomar en consideración a la hora de en primer lugar pasar el primer trámite y en segundo lugar de continuar con el trabajo son una serie de garantías jurídicas propias del sistema parlamentario que nosotros tenemos

es a través de los grupos parlamentarios y reciben el nombre de proposiciones de ley como todos ustedes saben también señorías las proposiciones de ley en un sistema digamos normal o habitual pues son aquellas que utilizan los grupos de la oposición y además son proposiciones de ley

que implican alguna serie de cambios iniciativas etcétera pero que evidentemente

un cierto acuerdo en la cámara si fuera posible pero sobre todo

y aquí salta a la vista o llama la atención la vía que ha empleado el gobierno el gobierno vasco se reunió con los grupos parlamentarios aquí presentes todos lo sabemos

la señora garamendi y su equipo nos llamó a todos los grupos parlamentarios sondeándonos un poco indicando la

no desvelo nada porque esto se ha contado por los propios interesados ante los propios medios de comunicación

a la hora de emprender una tarea de estas características y bueno lo que ha sucedido finalmente es que

yo creo que esto es muy importante y sobre todo reivindicar esta institución este parlamento como el órgano no solo de control al gobierno sino también el órgano en el que se lleven a cabo

y las discusiones legislativas con todas las garantías por qué ha hecho esto el gobierno pues es evidente para

es que si en el futuro se plantea un recurso de inconstitucionalidad que a lo mejor no viene por parte

a lo mejor no viene por parte de cincuenta diputados cincuenta senadores a lo mejor sí es que a lo mejor de quien viene es en un control que se llama incidental en el transcurso de un procedimiento judicial a lo mejor es que una empresa que recurra a lo mejor un particular un afectado en el transcurso de un procedimiento judicial considera

pues es inconstitucional y plantea lo que se llama un incidente de inconstitucionalidad ante el tribunal constitucional con lo cual yo creo que estos informes jurídicos

el sistema o el proceso legislativo como implícitamente parece que reconoce el gobierno pues no es así y yo creo que son muy necesarios yo creo que son tremendamente necesarios

yo creo que hay que dejar constancia otra cuestión y es que todo lo que ha sido la gestión digamos jurídico institucional de la pandemia pues ha dejado en españa muchísimo que desear

al señor lehendakari además aquí presente ni a su gobierno esto no es culpa

por parte del gobierno central por parte del gobierno de la nación gobierno apoyado en coalición por dos grupos aquí representados

desde fuera parlamentariamente también por el propio partido nacionalista vasco y otros grupos y hombre en primer lugar

violentando violentando lo que es la legislación sobre el estado de alarma seis meses para evitar eso de tener

y luego en todo este periodo de tiempo el gobierno central ha sido incapaz de presentar un proyecto de ley también en el ámbito central en el congreso de los diputados que regulase este tipo de cuestiones que actualizarse la vieja legislación del año ochenta y seis para el control

parlamentario del partido nacionalista vasco también se lo ha afeado y con razón al gobierno estoy de acuerdo con el señor esteban se lo ha afeado es que ha tenido tiempo de hacerlo oiga y no lo ha hecho

el gobierno no sé si por la situación electoral que haya en este momento en españa por la que venga lo que sea pues ha dicho que no piensa prorrogar el estado de alarma y claro ahora nos entran a todos las prisas no se puede gestionar una pandemia

en cualquier otro sistema parlamentario y sobre todo presidencial se le sometería probablemente a un proceso

hace este tipo de dejación de funciones eso para empezar y luego en segundo lugar tomemos ejemplo de lo que han hecho otros estados europeos en alemania

el que organice una serie de medidas una serie de medidas comunes

los que ejecutarán esas medidas pero hay que pactar hay que llegar a un acuerdo que sea razonable sensato y constitucional sobre cuáles son esas medidas comunes que hay que adoptar eso es lo que se ha hecho en alemania por ejemplo

qué es lo que está pasando en españa pues que claro con la excusa y es una buena excusa política yo se lo reconozco a los dos grupos del gobierno me cuesta un poco ver cómo el psoe la defiende pero en fin

los miembros del pnv de este gobierno ante la dejación de funciones nosotros vamos a aportar

el argumento político que hoy nos está exponiendo aquí sobre todo antes en su intervención el señor tellería

entre gestionar y gobernar hay una gran diferencia y es una diferencia

esto no es una situación de gestión esto es una situación de gobierno

de los gobiernos autonómicos y se exige altura de miras por parte del gobierno central y esto es algo que nos va a pasar factura a todos este tipo de gestiones

pues diecisiete islas distintas dentro de españa prácticamente diecisiete reinos de taifas prácticamente pues diecisiete regímenes distintos cuando el problema es similar y sobre todo

la vida más normal posible a los ciudadanos y la situación más normal posible para que también los agentes económicos y sociales puedan desarrollar su actividad y no se pare

todos los miembros de este parlamento y todos los grupos podemos estar de acuerdo en el fondo de la cuestión que es necesario adoptar medidas evidentemente pues claro que hay que adoptar medidas y claro que habrá que adoptar medidas autonómicas a lo mejor con la forma de ley a lo mejor con la forma de reglamento aquí en euskadi por supuesto pero lo primero que hay que hacer es respetar el ordenamiento jurídico

que estaban incluso por la labor de apoyar esas propuestas que se han hecho recientemente en el congreso de los diputados

la primera responsabilidad que tiene todo estado todo país toda comunidad autónoma y todo gobernante todo esto ya lo sabemos señorías

mire nosotros vamos a votar en contra por razones de forma y razones de fondo las razones de forma ya las hemos mencionado antes una

que viola directa no que afecta que se refiera a derechos fundamentales

aparte del contenido que se ha propuesto en esta ley tendría que ser aprobado por ley orgánica

a lo mejor hay parte del contenido que desborda el ámbito competencial

para luego pues un trámite de enmiendas o incluso en comisión pero lo importante en este momento es dejar claro

viene coja esta ley viene coja porque le falta esos informes jurídicos y eso es algo que nosotros criticamos cualquiera de los grupos que está aquí en la posición contraria lo haría los dos grupos que sustentan al gobierno si lo harían en caso contrario es decir lo criticarían igualmente como de hecho lo han hecho en el congreso de los diputados como de hecho yo les he visto hacer en el congreso de los diputados y además con razón

en cuanto a las cuestiones de fondo tampoco voy a aburrir a sus señorías con un análisis pormenorizado artículo por artículo pero hombre sí me gustaría destacar que es una ley que incluye unos contenidos que mezclan la situación esta de alarma con un estado de alarma al mezclar esas situaciones

le da fuerza de ley a una serie de medidas lo cual es muy cómodo para un gobierno desde el punto de vista jurídico porque en la actual situación de estado de alarma señorías como ya saben

nosotros como particulares asociaciones empresas instituciones tienen la posibilidad de recurrir a la justicia ordinaria a un juez ordinario como de hecho ha pasado en el caso de la hostelería

si se introduce en una ley el efecto es que ya no podemos recurrir directamente ante un tribunal ordinario para contestar eso a un tribunal ordinario pero ya el proceso de anulación de esas medidas sería muchísimo más lento porque eventualmente tendría que intervenir

muchísimo tiempo por tanto lo que puede parecer sobre el papel venga es que lo elevamos a rango de ley ya pero aquí lo que se está buscando es una argucia procesal eso por una parte

un contenido distinto a lo que es el principio de precaución por cierto

se mezcla en algunos casos determinados lo que es la declaración de emergencia con lo que es la atribución de la dirección del tema de protección civil

a diferencia de lo que ha dicho el señor tellería con el que insisto comparto el fondo del asunto es necesario que exista un armazón jurídico

con el objetivo final o coincidiendo con la esencia discrepo

esta ley no es imprescindible y urgente como han dicho los grupos que apoyan al gobierno no es ideal y sobre todo tampoco tiene vocación de consenso

unos mínimos intercambio de pareceres entre los grupos de esta cámara y los miembros del gobierno

además realizado insisto realizado por el gobierno no realizado por los grupos parlamentarios esto puede parecer una cuestión menor pero es que en el documento que circularon

consejera ni siquiera se molestaron en borrar la huella digital aparece como autor del documento el director de desarrollo legislativo es que aparece directamente su nombre nombres y apellidos por cierto hombre

este parlamento se merece por lo menos que cuidemos las formas

por cuestiones de fondo insisto nosotros lo que creemos es que es necesario que en esta cuestión tan seria

creemos que lo que hay que hacer en primer lugar es plantear una reforma de la legislación nacional plantear una reforma de la legislación nacional y luego a partir de ahí pues sí

y que a nivel autonómico se establezca por los desarrollos que sean necesarios pero si empezamos esto al revés por otra parte como tantas veces se hace en este estado autonómico y de ahí vienen luego las dificultades jurídicas esto

no va a añadir seguridad jurídica más bien todo lo contrario lo que va a hacer es añadir inseguridad jurídica inseguridad jurídica por eso nos vamos a oponer esta ley no ha sido capaz decía el señor tellería que es una ley que surge con la vocación de consenso pues hombre ha sido incapaz de atraerse a ninguno de los grupos o sea ninguno de los grupos apoyará la toma en consideración

evidentemente hoy la votación todos sabemos cuál va a ser la aritmética parlamentaria y las mayorías que hay en esta cámara harán que la toma en consideración salga adelante pero hombre lo que es muy importante en el ámbito parlamentario que es la capacidad de persuasión a los grupos de la oposición yo creo que deja mucho que desear o como se suele decir tiene muchísimo margen de mejora en este sentido ningún grupo va a apoyar especialmente o específicamente la toma en consideración yo creo que eso

reflexionar sobre la importancia de que una ley de esta magnitud

el trámite parlamentario en estas condiciones digo que no he sido además el único que ha criticado esta ley

algún colega también compañero profesor de derecho constitucional

a través de la prensa unas críticas muy importantes a esta ley críticas muy importantes no críticas

y tal y luego ya en el trámite parlamentario pues ya lo arreglaremos hombre es que no se puede hacer así

yo no digo que tengamos que previamente a presentarlo pactar hasta la última coma evidentemente porque eso corresponde al proceso parlamentario

unas líneas generales sobre todo cuál es el eje central y cuál es el ámbito en el que nos vamos a meter para regular y eso es importante y eso no se ha hecho y eso no se ha hecho por tanto

por eso nosotros votaremos en contra de la toma en consideración de esta ley y por eso nosotros continuaremos lógicamente con el proceso parlamentario

terminar mi intervención recordando lo que decía al principio nosotros votamos en contra de esta ley porque pensamos

porque pensamos que esta no es la forma de proceder parlamentariamente ni jurídicamente estamos de acuerdo

también global pero no se puede empezar la casa por el tejado hay que empezar estableciendo unos criterios comunes y a partir de ahí que las comunidades autónomas vayan desarrollando su

pero esa es nuestra posición muchas gracias eskerrik asko gordillo jauna erantzunen txandara pasatuz euskal sozialistak

turno he dicho que vengo a hablar de lo que podemos hacer desde este parlamento para combatir con seguridad jurídica a esta pandemia

que nos exceden pero lo que tampoco voy a hacer es rehuir ningún debate se ha venido hablando mucho durante estos últimos días y se ha hecho también en estos

nueve de mayo que es donde ustedes saben que vencería el estado de alarma

dijo claramente que se tienen que dar las condiciones por lo tanto vayamos paso a paso vayamos paso a paso y veremos si se cumplen o no veamos cómo va por ejemplo

absolutamente claro absolutamente claro que se adoptarán las medidas correctas como ha sido así hasta ahora

con este tema como con todos los temas que tienen que ver con la lucha contra la pandemia hay demasiado ruido político

ciento cincuenta y cinco en cubierto cuando se decía que la legislación ordinaria era suficiente pero lo hay ahora también

con presidentes autonómicos del partido popular sus compañeros de bancada que dicen que sí o sí se tiene que prorrogar el estado de alarma cuando el partido popular ni siquiera apoyó el estado de alarma que hoy dicen que hay que prorrogar sí o sí y por cierto

el señor maroto que el partido popular votaría en contra de una prórroga del estado de alarma así que yo le voy a decir una cosa que se aclaren

nosotros estamos convencidos de que el gobierno de españa tomará la mejor decisión para garantizar

se aclaren y de una vez por todas digan qué quieren y se comprometan con ello pero este asunto

no se va a decidir en euskadi no se va decidir en este parlamento

nosotros tratamos de garantizar la mayor seguridad jurídica para la toma de decisiones en la lucha contra la pandemia con estado de alarma o sin él y esa es la razón de esta ley decía el señor hacía una crítica de forma es decir proposición de ley urgente achacándonos que nos queremos saltar los procedimientos y de fondo que excede al ámbito competencial y que esto

constitucional y yo le tengo que decir señor gordillo que por mucho que quiera usted disfrazar en razones jurídicas

su postura simplemente responde a una estrategia política perfectamente definida incluso antes de saber el contenido de esta ley

yo también voy a jugar a los oficios ekain rico humilde abogado

las cuestiones que demuestran que ustedes tenían adoptada esta decisión antes de conocer

veintiseis de marzo once cuarenta y cinco de la mañana el grupo socialistas y el grupo nacionalistas vascos registran ante esta cámara la proposición de ley

y que duró más o menos unos veinte minutos y en esos momentos es cuando mandamos el texto de la ley a los miembros de la prensa y a los miembros

de los grupos parlamentarios por cierto no a usted no a usted pero

veintiséis de marzo doce y treinta y seis estábamos en la rueda de prensa el señor gordillo interpela

y le dice que presentamos como proposición de ley para evitar los informes de la cojua que lo hacemos por el procedimiento de urgencia

y que esto iba a acabar en el tribunal constitucional doce y treinta y seis

y ya tenían los argumentos que usted ha utilizado hoy aquí para defender su voto en contra

es incoherente porque usted representa al grupo popular ciudadanos usted es de ciudadanos pero representa al grupo popular ciudadanos y para escenificar eso además dieron una rueda de prensa ayer conjunta para decir que todos van a una como un solo hombre me parece

este es el expediente del instrumento jurídico que ha utilizado

en galicia para llevar a cabo su denominada

proposición de ley urgente proposición de ley urgente el mismo que aquí

sus compañeros del partido popular se han saltado la seguridad jurídica están cercenando los derechos de la oposición que es lo que hoy nos ha dicho aquí que estamos haciendo por utilizar este trámite por qué en galicia sí y en euskadi no igual esa es una pregunta a la que tendrán que responder pero es que además

como saben están recurridas ante el tribunal constitucional sabe por qué

a cualquier comunidad autónoma parece que sus compañeros del pp en galicia

la mayor seguridad jurídica en la toma de decisiones pero en euskadi no todo muy coherente todo muy coherente nosotros estamos abiertos a todos los debates jurídicos yo personalmente me comprometo a ello pero en la ponencia

en la ponencia como le ha dicho en mi compañero luis javier tellería una ponencia que si fuera por su voto no se iba a constituir porque van a votar en contra

todo absolutamente coherente nosotros estamos abiertos a mejoras y además queremos oír lo que van a decir el resto de los grupos parlamentarios en

estaría muy bien que abandonen posturas prefijadas y estaría muy bien que como hemos visto dejen atrás las incoherencias nosotros estaremos esperando porque creemos que la lucha contra el coronavirus es una lucha de todos lo único que le pedimos es que tenga esa vocación

pero voy a empezar diciendo que me pregunto qué se dicen ustedes cuando están reunidos cómo explica el señor rico el desdén y la total falta de palabra de su jefe el señor sánchez porque supongo que ambos saben señor rico y señor tellería que estamos aquí en parte

ley para dotar a las autonomías de herramientas legales para gestionar la pandemia ni una coma se ha escrito en la bancada socialista seguro que saben por qué acusa a la oposición muy graciosamente de estrategia política y lo suyo qué es señor rico me lo quiere explicar creo que lo suyo es siempre estrategia política desde el principio

por otro lado el pnv obsesionado desde el primer día con la soberanía y el autogobierno también de una pandemia que lo desborda que le supera que es nacional y global repito y que ha demostrado no tener capacidad para mejorar nos llevamos a hablar de paraguas legal y de esta forma

el bien porque el tribunal superior de justicia del país vasco no frenó sus pretensiones por considerar que no tiene competencias sino porque habían hecho las cosas mal

muchas dudas plantea su propuesta de ley desde este punto de vista constitucional y los servicios jurídicos de vox ya están en ello en previsión de que ustedes se empeñen en aprobar

para limitar derechos fundamentales repito derechos fundamentales de las personas sin control y sin rendir cuentas y resumo

como son contrarias a la constitución las pretensiones del señor lehendakari su rodillo ya está preparado imponen una tramitación de urgencia de una proposición de ley que debería ser proyecto estamos preparados por si fuera necesaria repito la intervención de instancias judiciales su único objetivo es liberar al gobierno vasco del necesario control judicial al que debe someterse su objetivo

de hacer esa que tan buenos resultados nos ha dado y que son expertos además en gestión de crisis como hoy nos explican además o no nos han explicado mejor dicho porque euskadi

mucho peor que cualquiera de las regiones limítrofes esta proposición es consecuencia del desdén del gobierno español y de una decisión judicial que nada ha gustado a un ejecutivo
que además ha demostrado una fatal incompetencia e incapacidad para gestionar esta crisis sanitaria económica y social eskerrik asko martínez andrea

muchas gracias señora presidenta bueno el debate ha ido un poco por donde todos veíamos en lugar de hablar específicamente de lo que es la ley de lo que es el trámite parlamentario en sí acabamos con

políticas son más fáciles ciertamente lo que pasa es que yo creo que este debate es muy serio y sobre todo no es un debate fácil tampoco mire ha utilizado usted una frase al principio que me ha encantado que por cierto de margaret thatcher

lo cierto es que yo creo que sí lo ha rehuido porque hombre está en una situación complicada yo lo entiendo no voy a profundizar mucho en la cuestión pero yo entiendo que está usted en una situación complicada porque su gobierno el gobierno que lidera su partido político en madrid pues es el responsable de que nos encontremos en esta situación y yo entiendo que eso es una incomodidad con sus socios de aquí que son los que con los que conjuntamente hay que gestionar ciertas cuestiones yo en ese sentido mire me solidarizo

con ustedes ni con nosotros sino que no están siendo leales con la ciudadanía yo me solidarizo con el señor lehendakari aquí presente en ese sentido dicen ustedes

no han hecho más que aportar confusión ustedes es que quien aporta confusión aquí desde el principio ha sido el gobierno central el partido socialista sobre todo en madrid pero si es que lo ha dicho hasta lo han dicho reputados personalidades

que añadir confusión y efectivamente ha citado usted que

al señor azpiazu aprovecharon ustedes para hacer una rueda de prensa

pudiéramos conocer alguno de los contenidos y hombre me pareció una cosa como poco yo no voy a decir fea pero hombre poco elegante parlamentariamente presentar ahí una proposición de ley de un día para otro cuando más o menos se nos había dejado a entender que esto era

antes de presentar una proposición de ley en estas condiciones yo hoy ha hablado también por cierto usted

en debates muy jurídicos para no cansar a sus señorías el caso gallego es un poco distinto sobre todo porque

tampoco lo voy a rehuir pero es curioso porque lo que ha hecho el presidente del gobierno es utilizar el privilegio que le concede la constitución y la ley orgánica del tribunal constitucional que es

el presidente del gobierno estaría genial que se aprobara esta ley que luego la recurra el propio presidente del gobierno eso ya sí que sería el esperpento

una ley autonómica tiene el privilegio de solicitar la suspensión automática de la ley que es lo que hace el gobierno siempre que la recurre yo por eso quiero que las cosas queremos que las cosas se hagan bien y esta no es la forma de hacer las cosas bien por eso les ofrezco a los grupos del gobierno que retiren esta ley

con el gobierno central y que hagamos luego entre los grupos de esta cámara una negociación para presentar conjuntamente consejera conjuntamente una proposición de ley que sirva para desarrollar nuestras competencias autonómicas estirarlas hasta el máximo como suelen decir ustedes y desarrollar aquí lo que es conveniente hacer una vez que haya unos principios generales como pasa en los sitios donde los políticos ponen los intereses de la ciudadanía por delante de todo que es como en alemania por eso les insto que retiren esta proposición de ley se negocie con el gobierno central y se negocien unas condiciones mínimas a nivel nacional y luego presentemos conjuntamente

pero que lo hagamos con calma y que lo hagamos para que tengamos efectivamente aquí un desarrollo legislativo necesario por eso nosotros hoy hemos pedido

porque entendemos que a pesar de los comentarios que pueden hacer ciertos grupos
esto un problema muy serio y esto es un problema de todos muchas gracias eskerrik asko gordillo jauna

berandu samar datorrela la verdad es que nos hubiera gustado ciertamente nos hubiera gustado que esta propuesta hubiera llegado antes

de otra manera cuando menos y ya se ha explicado profusamente aquí a través del gobierno y no de los

que hubiéramos contado con los informes preceptivos que en este caso son necesarios pero bueno la ley la propuesta la proposición de ley nos llega hoy

en pleno repunte de la pandemia con los hospitales llenos con

con una cita web para la vacunación de nuestros mayores que obviando la brecha digital además funciona a veces sí a veces no

muchas cosas bastante mal pero no es el momento de hablar de cómo se está gestionando la pandemia es el momento de hablar de esta ley de

arduratsu jokatuko dugu no vamos a ser una oposición irresponsable nunca y tampoco lo vamos a ser en esta ocasión y tenemos que asegurarnos que esta ley que vaya a aprobarse no sea un papel vacío sino que para algo que blinde derechos que se han citado para hacer frente a la pandemia

que la ocasión lo requiere precisamente por eso por todo esto nos hemos abstenido guk ondo irakurri dugu zuek aurkeztutako

la gestión ni la acción de gobierno de una manera efectiva

el texto que nos han presentado para que podamos decir que tenemos la ley antipandemia vasca no su ley antipandemia por eso

a que acepten este reto a que nos pongamos a trabajar

no cojan el camino fácil que es el de tirar de mayoría absoluta

sin acordar por eso decía nuestra abstención es una abstención crítica

abstentzio kritikoa baina proposatzailea da gurea hori bai nos conocemos por favor no tomen esta abstención como un sí no nos gusta

queremos consensuar un texto mejor si no somos capaces de llegar a un texto mejor entre todos

y no es lo que quisiéramos eskerrik asko eskerrik asko gorrotxategi andrea

ekin diolako krisi honi eta egiteko modu zabarraz eta lege proposamen honetan ere hori nabaritzen da llevamos un año de pandemia en el que no se ha planteado ningún cambio estructural ni respuesta que haya ido más allá de restringir y culpar permanentemente a la ciudadanía ez zarete gai izan elkarlanerako marko adostu

estamos ante una propuesta manifiestamente mejorable tanto desde el punto de vista jurídico político como desde luego desde el punto de vista sanitario y por cierto y por cierto también es una chapuza lingüística importante euskarazko bertsioa irakurri besterik ez dago

la pandemia con sus propios medios es la mayor confesión de impotencia es el mayor reconocimiento

todos los instrumentos necesarios para cuidar a la gente y que incluso

al máximo los que tenemos y ya que demuestran esta impotencia abiertamente

llama la atención que no haya ninguna mención en toda la ley ni tan siquiera en la exposición de motivos ni a la oms ni al centro europeo de control y prevención de enfermedades nada tratándose de una ley contra la pandemia pero tampoco

y sociales de la crisis sanitaria ni a la necesidad de reforzar los servicios asistenciales y de salud pública se olvida todo eso y sin embargo se eleva a categoría lo que no debería de pasar de ser un reglamento como es establecer distintos escenarios y niveles con números muy concretos y esos escenarios y niveles además no concuerdan para colmo con la evidencia científica disponible actualmente eta ez ditu aipatu ere egiten beharrezkoak diren beste hainbat neurri

herritarrak zigortzeko pentsatua casi un tercio de la ley anticovid es para las sanciones sanciones contra la ciudadanía ha sido una constante de este gobierno sacudirse toda responsabilidad en la gestión de la pandemia y echar la culpa siempre a otros

no hubiera permitido o no hubiera fomentado y nos llama también la atención que se acuda a la ley mordaza en contra de lo aprobado por este parlamento como soporte jurídico para la toma de medidas restrictivas punitivas

ere como decía la situación es delicada el número de contagios es muy elevado

la saturación del sistema hospitalario también es una evidencia

con situaciones de los críticos semejantes a la primera ola y con

de las hospitalizaciones o incrementos de seiscientos pacientes en una semana también en los hospitales de la comunidad autónoma del país vasco

ni navarra que recientemente nos pasaba en número de contagios y en algunas tasas preocupantes

saber las razones por las que estamos aquí después de tener unas medidas tan restrictivas las más restrictivas que se pueden adoptar y que está claro que no están dando resultados es necesario conocer las causas de estos repuntes dónde están los focos

efectividad dónde están los focos para detener los contagios y como

no se está realizando un verdadero análisis epidemiológico de dónde se están produciendo los contagios porque si no las soluciones

se mejorarían y por lo menos atinaríamos en las soluciones y parece que ahora no se está haciendo

no sabemos tampoco por qué se permiten grandes concentraciones cuando se sabía perfectamente los efectos negativos que luego llevarían después

que son los que estamos teniendo ahora en las altas incidencias que luego tienen una repercusión como bien nos explicó ayer la consejera en los hospitales tanto en los ingresos en planta como en las uci

y creo que en eso quiere hacer una referencia la iniciativa que hoy nos presenta eh bildu sobre el refuerzo de indicadores centinela para dar respuesta con eficacia la epidemia en la comunidad autónoma del país vasco nosotros nos parecían algunas cosas interesantes de esta iniciativa

una enmienda a la totalidad a la misma yo no me voy a referir a la iniciativa concreta de eh bildu porque la ha explicado la señora

sus iniciativas pero creo que en algunas cuestiones sí que creo que era mejor también traer a colación

no solo de la gestión de la pandemia sino la de la propia gestión del proceso de vacunación creemos que hay que reforzar

vinculados con algunas cosas o cuestiones que se plantean en la iniciativa de la proponente nosotros consideramos que hay que reforzar el servicio de vigilancia epidemiológica dependiente de la salud pública es algo que lo hemos reiterado en muchas ocasiones y prácticamente en todos los debates

y que en ese sentido se tiene que dotar de los recursos necesarios para garantizar las prioridades en materia del sistema de información epidemiológica susceptibles de orientar adecuadamente la toma de decisiones posteriores para nosotros esto es absolutamente prioritario

también instamos al gobierno vasco a priorizar la utilización de las pruebas diagnósticas disponibles en aquellos colectivos que representen un mayor riesgo de transmisión

eso también es algo que sistemáticamente lo hemos propuesto en nuestras iniciativas por otra parte también creemos que hay que instar al gobierno vasco a garantizar que los criterios que se utilicen en la elección de las pruebas más adecuadas así como de las poblaciones que sean determinadas por los especialistas

y y no en base a intereses políticos y mediáticos es decir que estas poblaciones que se someten a estas pruebas sean elegidas

por los especialistas de microbiología y epidemiología por otra parte algo que también lo hemos reiterado en muchas de nuestras propuestas es que se disponga que los laboratorios dispongan de

para que la secuenciación permita un conocimiento preciso de la distribución de las

creo que ello también es otro de los aspectos importantes y finalmente instamos

muestra saliva que presente una elevada sensibilidad y ofrecer una mayor aceptabilidad y comodidad en especial para nuestras personas mayores uste dugu

gracias señora presidenta comenzaré haciendo una síntesis de la que va a ser mi intervención nosotros coincidimos con el grupo proponente en que la secuenciación del coronavirus es una herramienta importante para identificar

nuevas pero entendemos que esta secuenciación se debe hacer conforme a los parámetros que se han establecido para ello por las autoridades sanitarias y epidemiológicas y no por los criterios que con toda la buena voluntad del mundo y vaya por delante que no lo pongo en duda pueda tener cualquier grupo

en efecto como ha dicho la señora ubera hemos hablado en no pocas ocasiones sobre esta cuestión y de hecho se han formulado diversas solicitudes de información documentada al respecto

el pasado catorce de enero el propio grupo proponente preguntaba por estas cuestiones al departamento y posteriormente registró la pnl que hoy debatimos antes de recibir

con la remisión a esta cámara a petición del grupo popular ciudadanos del específico protocolo de secuenciación genómica en la vigilancia del coronavirus aprobado en enero de este mismo año

y por la comisión de salud pública del consejo interterritorial tal y como se informa en estas respuestas desde el comienzo de la pandemia

que estudia los patrones de transmisión de covid diecinueve combinando datos procedentes de la secuenciación del coronavirus sars cov dos con información clínica y epidemiológica de los pacientes hasta ahora se han caracterizado más de mil secuencias representando el cero coma setenta y tres por ciento de las muestras positivas

así el país vasco aporta un número importante de muestras a este proyecto en el que se han secuenciado por el momento seis mil seiscientos ochenta y nueve cepas de sars cov dos a nivel estatal con el objetivo de identificar

se han implementado varias estrategias el establecimiento de un sistema de vigilancia microbiológica activa a través de un

diseño de un protocolo específico para la detección de casos epidemiológicamente sospechosos identificados a través del sistema de rastreo de casos de la red de vigilancia epidemiológica el estudio específico en colectivos en los que se observa una alta tasa de transmisibilidad del virus y también el estudio de brotes

conocen por la información que todos hemos recibido en esta cámara el pasado veintidós de enero se aprobó un protocolo específico para la integración de la secuenciación genómica en la vigilancia del coronavirus

un protocolo que tal y como se recoge en el propio documento está en constante revisión en función de la evolución y nueva información científica que se disponga de hecho ya ha sido actualizado una vez por qué se hizo este protocolo bueno pues el diecinueve de enero la comisión europea publicó un comunicado

porque tal y como señalaba el centro europeo de prevención y control de enfermedades se había detectado que solo un estado miembro solo un estado miembro estaba analizando más del uno por ciento de las muestras mientras que todos los demás no están secuenciando lo suficiente incluso no estaban secuenciando en este sentido tres días después

en españa aprobamos el protocolo de que venimos hablando en el que se propone analizar un número de muestras que se sitúen alrededor del uno o dos por ciento de los casos

hasta llegar al objetivo propuesto por la unión europea que es entre el cinco y el diez por ciento y lo que es más importante en este protocolo se establece un procedimiento concreto conforme a las directrices que el propio centro europeo de prevención y control de enfermedades ha desarrollado estableciendo incluso directrices específicas

a medida de cada una de las variantes porque dentro del protocolo se establecen los objetivos los puntos clave a tener en cuenta para la integración de la secuenciación en los sistemas de vigilancia y también el procedimiento a seguir y los casos y situaciones en las que se indicará la secuenciación

de muestras a secuenciar por cada comunidad autónoma también en euskadi y lo cierto es que analizándolo poco o nada tienen que ver con lo que hoy nos propone el grupo proponente

buena voluntad pero lo cierto es que a nosotros nos parece más razonable seguir las directrices de secuenciación que marcan los expertos del centro europeo de prevención y control de enfermedades

y planes de preparación y respuesta de la comisión pública del consejo interterritorial que ponernos a cambiar esas directrices según las indicaciones de ningún grupo político pero de ninguno ni siquiera del nuestro creemos que es algo de simple lógica y que puede entenderse perfectamente y realmente

conforme a los criterios que se han establecido por esas autoridades sanitarias y epidemiológicas con el objetivo de analizar la presencia y evolución de las diferentes mutaciones del virus

o colectivos en los que la evolución de los contagios así lo aconsejen
conforme a esos criterios epidemiológicos nada más y gracias eskerrik asko rico jauna

egun on berriro guztioi sailburu andrea legebiltzarkideok sé que soy persistente como el covid

sé que soy persistente como el covid pero no dejaré de pensar que pnl de este tipo conllevan un contenido excesivamente técnico que al menos a mí

me desborda a pesar de mis extensos conocimientos más derivados de mi edad

a partir de aquí no voy a hablar de lo que realmente se ha hablado

porque son dos cosas totalmente diferentes bien en el fondo este es un debate de los que nos trae la señora ubera porque algún epidemiólogo le ha contado lo que él piensa sobre mejoras en la gestión y trazabilidad del covid diecinueve

hablemos con otros epidemiólogos sobre cuánta razón tiene o no

porque son temas tan técnicos y específicos que de ello solo pueden hablar con propiedad quienes saben mucho del tema y no solo con un cursillo necesitan

nosotras y nosotros reconozcámoslo hablamos de oídas y la realidad es que más que probablemente

porque además de tener una idea de mejorar la gestión y el seguimiento de la pandemia probablemente no pertenecen a los órganos de gestión y seguimiento de la pandemia mientras

los epidemiólogos que se encuentran al frente de la gestión y seguimiento de la pandemia pero aun y todo en caso de que de verdad yo fuera un vago redomado y ni siquiera les hubiera dedicado un minuto a consultarles traería aquí el modelo de gestión y seguimiento de la pandemia que ellos vienen dirigiendo y supervisando y por qué digo esto por algo muy sencillo

porque ellas y ellos son los que más información tienen al momento y ellas y ellos son quienes tienen la misión

a quiénes o cuándo ellas y ellos son quienes toman las decisiones de las diferentes secuenciaciones que haya que hacer cuándo y cómo y ellas y ellos son los que cuentan con personas asesoras ellas y ellos son quienes mantienen el contacto con otros organismos especialistas de europa y del mundo

son quienes repasan información técnico científica permanentemente y la contrastan con otras y otros colegas en puestos asimilados todo esto hace

son las que parecen más adecuadas y puede parecer que es un acto de fe

pero sería en cualquier caso el mismo acto de fe que nos plantea aquí la señora ubera respecto a lo que piensan

sin que esto tenga que servir como demostración de nada voy a bajar por un momento al escenario técnico en el que la señora ubera desea que se dirima este debate

seguiré creyendo que este foro es para otro tipo de debates salvo que este parlamento lo constituyamos en sede de un congreso permanente de epidemiología en primer caso

coronavirus genera de vez en cuando variantes permanentemente variantes pero hay algunas que son especialmente significativas porque acumulan

y los epidemiólogos que son muy listos para la epidemiología no lo son tanto para denominar estas cosas

luego hay otras variantes dentro de las interesantes que ellos les llaman en

que además de acumular mutaciones tienen características especialmente alarmantes para la salud pública que yo resumiría en el triple eje velocidad daño y resistencia es decir tienen más transmisibilidad más patogenicidad

en este sentido y como preocupantes que no solo interesantes hay

a partir de aquí qué hay que vigilar qué tenemos de qué tenemos que ser centinelas pues mire para empezar hay que seguir las directrices de un documento llamado integración de la secuenciación genómica en la vigilancia sars cov dos

siglas ecdc no se confundan con acdc ecdc

y que lo aprueba la ponencia de alertas y planes de preparación y respuesta de la comisión de salud del consejo interterritorial este documento

de una manera planificada y representativa de la sociedad en un uno o dos por ciento de las muestras positivas y ahora aclaremos cómo se vigilan las cosas aquí en euskadi por un lado se vigilan las tres preocupantes lógicamente a partir

y en este caso en euskadi se están haciendo en un porcentaje de más del cuarenta sino más del cincuenta por ciento de todos los casos nuevos la finalidad de esta vigilancia exhaustiva que es exhaustiva

sabemos que está instalada entre nosotros de una manera muy normalizada se informa inmediatamente a salud pública para una vez detectado con estos rastreos

la introducción y expansión de estas cepas y si fuera posible

porque esto es importante para que la vacunación avance lo más posible antes que estas nuevas cepas se extiendan ampliamente y puedan provocar algún problema

las nuevas aparición de nuevas posibles variantes de preocupación

mediante la secuenciación aleatoria de un uno o dos por ciento de los nuevos casos detectados que es lo que refería antes al citar la ecdc la finalidad en este caso es totalmente diferente en este caso se trata de colaborar en un esfuerzo mundial por detectar precozmente nuevas variantes de preocupación distintas de las anteriores

y otros organismos internacionales han solicitado encarecidamente a todos los países que secuencien aleatoriamente un porcentaje de los nuevos casos y que introduzcan

abierta a investigadores de todo el mundo y ahí

posible aparición de nuevas variantes de preocupación es una colaboración mundial en este análisis se ha encontrado de momento una variante

nigeriana que de momento es una variante interesante que podía ser pasar a ser preocupante como se ve

y permite detectar la circulación de variantes en todos los ámbitos incluidos los que usted señora ubera refiere en su pnl como es la atención primaria hospitalización

hospitalizados con infecciones graves brotes con alta tasa de ataque aumento rápido de casos sospechas de reinfecciones y de positivos en personas vacunadas

se centra en el ámbito sanitario particularmente y no por ejemplo en el de bomberos en mucho más útil no lo dude indagar de un modo universal en todos los posibles ámbitos de aparición del virus

seguimiento que mantiene el departamento de salud cumple con creces tanto las necesidades propias de vigilancia de variantes preocupantes como las de variantes de interés que superan las recomendaciones de los organismos encargados de la vigilancia epidemiológica nacionales e internacionales suponiendo una vigilancia muy estrecha sobre las variantes del virus con datos extrapolables a toda la población en general

por eso pensamos que nuestra enmienda que exige cumplir esos estándares es la manera correcta de trabajar en ese seguimiento de las nuevas mutaciones víricas su propuesta

que es lo que interesa y yo no le encuentro más sentido que el de la posibilidad de tener datos más exhaustivos

pero ahora el departamento de salud no está para tesis está para avanzar en el conocimiento y solución de esta pandemia no se pueden seguir trasladando debates tan técnicos

son los epidemiólogos al mando de las operaciones en euskadi en el estado y en europa los que han decidido actuar así y por algo será

no tiene tanta trascendencia porque es un tema tan específico y técnico que se le escapa al común de los mortales no podemos seguir trasladando un debate más ante la población porque seguimos desconcertando yo le pido que sugiera en la próxima pnl la celebración de un congreso de epidemiólogos de covid

todo abocado al fracaso por la imposición de medidas y criterios por parte de dos partidos que se han cerrado a aportaciones ajenas

a pesar de la que está cayendo con sus votos van a aprobar seguir haciendo

seguir corriendo detrás del virus seguir limitando la movilidad de las personas y seguir sin rastrear convenientemente ni positivos ni contactos estrechos por ejemplo para el rastreo de casos el gobierno vasco infrautiliza una aplicación concreta y digo infrautiliza porque desde el comienzo ha rechazado rellenar el apartado relativo al lugar de los contagios

en el metro me da igual que la gente vaya hacinada como si la mascarilla impidiese el cien por ciento

me pregunto qué pretende exactamente bildu con una propuesta así si esta proposición no de ley llevara el sello de mi partido de vox a bildu le parecería una aberración

aún ven en la imposición magníficas herramientas de hacer política

el fin justifica los medios y he de reconocer que el planteamiento del pp es sensato aunque introduce una variable que a mí me hace dudar que es el punto número cinco son meses en los que estamos viendo que gente que nada sabe se dirige a la ciudadanía como si hubiéramos hecho un master en epidemiología y son varios además los casos y muy significativos

que se echan las manos a la cabeza cuando analizan la forma de tomar decisiones que exigen estudios autocríticos sobre la gestión realizada para poder corregir errores estudios que nadie parece dispuesto a realizar quizás

las cosas serían de otra forma los resultados serían mejores de ahí que me cueste

sinceramente no creo que nos corresponda a nosotros tomar decisiones a este respecto ahora que si lo han basado en informes de expertos estamos dispuestos

un día más dinero malgastado de debate innecesario en este parlamento de teatro burlesco de quienes se dicen demócratas y son incapaces de debatir
de discutir y aún menos de acordar eskerrik asko martínez andrea

aunque yo coincido que aquí estamos para hacer un debate político y no un debate técnico desde luego a mí me parece que es un debate

pero también preocupante nosotros entendemos y entendimos cuando leímos la iniciativa de la señora ubera por su contenido tras la lectura del contenido que es una iniciativa que buscaba

al seguimiento y al control de la pandemia en ese sentido y sin ver totalmente necesarios algunos de los elementos que se proponen nosotros no hemos enmendado y vamos a votar

de las muestras y sobre todo en caso de colectivos concretos colectivos de contacto con el virus colectivos de mayor exposición como son

epidemiológico tenemos algunos matices con el tema de los cribados ya lo hemos expresado también en alguna ocasión

y sí echamos en falta la realización de otro tipo de cribados más específicos pero bueno esto ya lo hemos hablado en otras ocasiones y así lo hemos expuesto pero en líneas generales la iniciativa pensamos que puede ser

infección que precise ingreso hospitalario está vinculada a una mutación concreta o no la señora ubera ha hecho referencia a esto y es verdad hace unos meses escuchábamos de alguna manera decirnos por parte del gobierno que

que apenas existían y luego hemos visto la evolución son aspectos interesantes por lo tanto en nuestra opinión desde el punto de vista de la investigación médica desde luego y pensamos que no van en contra de los criterios establecidos por las autoridades sanitarias a los que hace referencia la enmienda del partido nacionalista vasco y partido socialista de euskadi los que ha detallado

el señor rico porque por lo que nosotros entendemos que en líneas generales la iniciativa que se nos presenta

que necesitará más recursos que necesitará más recursos no sé si ese es en realidad el fondo de las diferencias

de los grupos que sostienen al gobierno aunque tampoco vamos a votarla a favor ya que después de escucharles pues creo que entienden que ya se está haciendo

a raíz de esta iniciativa concreta respecto a la enmienda del partido popular ciudadanos de la señora garrido

nos parece acertada tenemos también matices con el punto con el último punto al que ha hecho referencia la señora martínez

debatimos con ella en este parlamento por cuestiones políticas pero nos parece acertada su iniciativa en algunos aspectos a nosotros incluso nos gusta más que algunos de la iniciativa original pero su enmienda señora garrido

yo sé que ustedes no han llegado a un acuerdo por cuestiones políticas ajenas al contenido de la iniciativa y al debate concreto

no voy a cuestionar las razones por las que ustedes entienden que pueden transaccionar o no con otros grupos lo que sí voy a aprovechar es para pedirles el mismo respeto

cuando decidimos por ejemplo no participar en un debate en esta cámara por las razones políticas que a nosotros nos parezcan oportunas yo me voy a abstener a su enmienda señora garrido pero tengo que decirle que la podía haber respaldado perfectamente incluso le voy a decir que si del voto de nuestro grupo hubiera dependido la aprobación de esa enmienda

hubiera sido un voto favorable de aquellos a los que su partido

especialmente los portavoces que han entendido que nuestra iniciativa en algunos de los puntos era precisa o ha tratado de ser precisa sí me voy a ceñir a explicar

el de la realización de las pruebas diagnósticas mediante muestra saliva

indicación o sugerencia de personas que están en este ámbito en el ámbito epidemiológico hay distintos estudios que están

al respecto de los diagnósticos salivares no invasivos que podrían proporcionar una forma de detección segura rápida

poco invasiva yo creo que estas son las claves en relación

en numerosos artículos científicos que muestran su apoyo a la realización

en el resto bueno pues hemos tratado de ser precisos y de ser coherentes sobre todo en relación

ahora todo lo que tiene que ver con reforzar el servicio de epidemiología

puedan presentar un riesgo de mayor transmisión por estar en una situación de mayor

epidemiológicos y por los técnicos

que son las que consideramos en este momento que son importantes indudablemente hay muchas otras pero también tendremos ocasión de

próximo jueves o el siguiente otra moción presentada por nuestro grupo que incide en cuestiones que también están de actualidad en estos momentos como es todo el tema de la red de rastreo de mejorar la red de rastreo para detectar

las cadenas de transmisión hacer también hincapié y priorizar a los

también otras cuestiones como mejorar todo lo que tiene que ser el llamamiento

esta semana problemas están ahí y no se pueden obviar y por lo tanto hoy me he querido centrar en estas cuestiones pero obviamente pues como este tema está como no podía ser de otra forma de actualidad

medios y las respuestas que se están dando y sobre todo subsanar

y que creo que el objetivo además es compartido que se acelere el proceso de vacunación

que tenemos que seguir haciendo la secuenciación de coronavirus y que tenemos que seguir avanzando en el número de secuenciaciones de ese coronavirus

es en el cómo es decir nosotros entendemos que tenemos que seguir las indicaciones de los expertos que en este caso como saben ha sido el centro europeo de prevención y control de enfermedades y la ponencia de alertas de la comisión

y es una cuestión fíjese previa incluso al posicionamiento político porque en este

permítame la expresión sobra o al menos no es que sobre pero no es tan relevante

sobre cómo lo tenemos que hacer y no pesa lo mismo que quienes están en el día a día

ya lo digo desde el ámbito de la propia unión europea como he comentado existe un protocolo y ese protocolo nace porque desde la comisión europea se da la alerta

señora ubera estaremos absolutamente de acuerdo que es poco es muy poco y con solamente tres días de

en el ámbito del consejo interterritorial la ponencia de se pone a trabajar y saca un documento

ha sido de febrero para trasladar

medios para hacer esas secuenciaciones que se han trasladado desde

y cuando yo les traslado aquí que nosotros lo que proponemos es que se haga así no es que estemos planteando algo involutivo

es seguir esos protocolos que en su propio documento establecen que se van modificando lo vuelvo a decir ya lleva una modificación

entonces estamos hablando de que sea un proceso evolutivo en el que esos parámetros puedan ir cambiando pero no por lo que decida me va a perdonar el partido socialista pero no por lo que decida el partido nacionalista vasco

ni eh bildu ni podemos ni vox porque en este caso

yo cuando hoy voy a votar en contra de su iniciativa lo hago porque no coinciden esos ámbitos y lo he dicho desde el principio entiendo la buena voluntad de su iniciativa porque además compartimos

ampliando pero es que en ese protocolo del que somos parte ya se va aplicando esa

el uno el dos por ciento si han leído el protocolo

se establece hasta un número de pruebas a secuenciar por la comunidad autónoma del país vasco y llegar a ese objetivo del cinco diez por ciento

de lo que ustedes plantean es como he dicho porque no coinciden porque ustedes

hay dos laboratorios que son los que se están ocupando cruces y donostia

rutinariamente el cincuenta por ciento de las muestras yo le he dicho solamente un país

solo un país de la unión europea llega al uno ustedes nos proponen cincuenta por ciento de las muestras el protocolo habla del uno dos

que se ha planteado la unión europea nos hablan de priorizar las muestras derivadas de

ámbito de no profesionales como podemos ser usted y yo pueda tener una lógica pero si nos vamos a las directrices que marca el centro europeo se dice precisamente lo contrario

ochenta por ciento procedentes de atención primaria y solo veinte por ciento de atención hospitalaria y me dirá explíquemelo no lo sé no lo puedo explicar es lo que quiero que usted entienda cuando yo subo aquí y le digo es que no lo puedo explicar

en que estos expertos del centro europeo de prevención

y le aseguro que por lo menos tienen mucha más formación que la que tengo yo que la que tiene usted y que la que tiene cualquiera de los que nos sentamos aquí en este ámbito tampoco vamos a echarnos piedras a nosotros mismos pero en el ámbito epidemiológico

que reconocer los cribados comarcales

que las muestras no deben proceder del mismo origen se dice

lo dice y dice que se realice la secuenciación de personas vacunadas y positivas en su iniciativa y en el protocolo se recoge pero fíjese se recoge y esto sí lo llego a entender me parece hasta bastante fácil de entender que es interesante recoger esa secuenciación

con la dosis completa y en el tiempo ya en el que haya podido hacer efecto esa vacunación

si esa infección ha superado el poder que tiene la vacuna bien pero como ve esto no es lo que dicen ustedes en su iniciativa entonces

lo único que le digo es que nosotros vamos a votar nuestra enmienda con ese carácter de ir evolucionando en el tiempo hacia más secuenciaciones pero conforme se dice por los
expertos epidemiológicos nada más y gracias eskerrik asko rico jauna

mahaiburu andrea mire si el debate es técnico político

ninguna teoría general ahora cuando ninguno de los parlamentarios que estamos aquí tenemos ni idea

político y cuando nosotros estamos hablando por oídas de lo que nos cuentan expertos estamos hablando más bien de un debate técnico otra cosa es que cuando un grupo de la oposición trae un debate

le voy a decir una cosa fíjese si el debate era técnico

que usted ha dedicado más de la mitad del tiempo más de la mitad del tiempo de su primera intervención a hablar de reforzar personal

eso no está en su pnl no está en ningún sitio de su pnl ha hablado

ha hablado de informar a la ciudadanía que tampoco está ha hablado de residencias de mayores tampoco está ha hablado de los diferentes criterios en uci que tampoco está es decir ha venido a hablar

porque esto no daba más de sí y la señora garrido ha hablado más de la mitad del tiempo de la

de la interpelación que le hizo el viernes pasado a la consejera sobre el exceso de medidas

concentraciones por el athletic de bilbao de luego ha leído su enmienda rápidamente

y ha dicho que la nuestra dice poca cosa por qué es que no sé por qué dice poca cosa

lo que dicen los expertos que hay que hacer insisto que este es un debate técnico por mucho que ustedes lo quieran convertir en otra cosa respecto a lo que dice

hay que hacer un mayor porcentaje es que a mí me gustaría saber de qué estamos hablando de qué estamos hablando porque la propia pnl original de bildu habla

de qué para las preocupantes o para las interesantes

pero como no lo han diferenciado pues no lo sé si estamos haciendo bien o mal porque de las interesantes se está haciendo lo que dice la fdc

habrá que aclarar qué es lo que están pidiendo insisto que es un debate técnico donde no sabemos ni lo que estamos diciendo puede decir más cosas el que ha estado más tiempo sentado con un experto y menos cosas el que ha estado menos sentado con un experto ese es un debate técnico o político

lo que voy a intentar es que centremos el tiro en donde tengamos que centrarlo y si quieren hablar de

pero cuando hay referencias técnicas estatales de euskadi internacionales que dicen cómo hay que proceder de una manera parece que yo entiendo que esos técnicos no son ajenos a lo que pueda pensar

y son expertos de verdad si intentamos empezar a diferenciar en expertos de verdad y expertos de mentira

treinta y cuatro contra beraz onartuta geratu da osoko zuzenketa

egun on berriro guztioi bien la situación del empleo público

a debatir la situación del empleo público en euskadi tiene en estos momentos una pésima radiografía en nuestra opinión y

pública y en la gestión política de los servicios públicos de este país sin un empleo público fuerte valorado

y adecuado a las necesidades de la ciudadanía no se pueden tener unos servicios públicos de calidad ni una administración a la altura de las necesidades

desgraciadamente es que tenemos un empleo público en nuestra comunidad autónoma caracterizado por todo lo contrario de lo que se necesita raquítico precario maltratado en muchas ocasiones y con una altísima temporalidad como conocen perfectamente

tenemos menos empleo público que la media de la unión europea también menos que la media del estado con una externalización de servicios y por lo tanto de empleos altamente elevados

trabajan vía subcontrataciones para administraciones públicas y empresas públicas vascas ninguna administración o empresa pública vasca se libra de las subcontratas perpetuas

se siguen adjudicando para servicios que son estructurales y que por lo tanto deberían ser asumidos por las administraciones públicas servicios de limpieza

informáticos la lista es muy larga y en alguna ocasión

enumerado muchas de estas trabajadoras y trabajadores han ganado juicios al gobierno vasco precisamente porque en el fondo desempeñaban

y del empleo público no se da únicamente a través de la vía de la externalización del personal sino también el personal interino o no fijo

década la temporalidad del sector público ya lo hemos dicho en muchas ocasiones y creo que nadie lo niega es un escándalo de unas cifras que ya eran elevadas de por sí a principios de siglo

se ha disparado en estos momentos al entorno o por encima del cuarenta por ciento en todos los ámbitos educación salud administración local foral

la administración de justicia o en educación es decir una situación de temporalidad estructural que es estructural generalizada

en muchas ocasiones tenemos la tasa de temporalidad más alta del estado español y de la unión europea

tenemos más temporalidad en el empleo público por esa razón desde elkarrekin podemos izquierda unida hemos presentado una iniciativa que busca la mejora de la calidad del empleo público

porque pensamos que es necesario mejorarlo para tener unos servicios públicos de calidad y también para dar un marco de seguridad seguridad laboral a las y los empleados públicos una iniciativa que se centra en origen

temporalidad por ser una de las cuestiones más escandalosas pero también más urgentes pero que aborda otras cuestiones necesarias para la mejora de la calidad del empleo público porque nos parece un todo el problema de la temporalidad se debería haber atajado hace tiempo pero no se ha sabido o no se ha querido atajar para nuestro grupo desde luego

del escaso interés que ha tenido el gobierno vasco los sucesivos

por garantizar unas plantillas consolidadas que permitan tener unos servicios públicos fuertes y a la altura como decía de lo que demanda y necesita la ciudadanía de este país como he mencionado anteriormente la temporalidad alcanza en euskadi en estos momentos

público muy por delante de la mayoría de comunidades autónomas y muy por encima de la temporalidad en el empleo privado aproximadamente diecisiete puntos por encima del sector privado y trece puntos por encima de la media de las comunidades autónomas en el conjunto del estado a estas inadmisibles cifras no se ha llegado de la noche a la mañana

a un devenir inevitable se trata de una apuesta estratégica de políticas que solemos denominar como neoliberales

quebrantan la calidad en la prestación de los servicios públicos los empeoran y de manera indirecta se favorecen así las opciones privadas y con ello viene el aumento de las desigualdades las cosas se han hecho realmente mal

un modelo de empleo público precario basado en nuestra opinión en dos patas una es esta de la temporalidad excesiva y abusiva

de subcontratación de servicios al sector privado un sector privado que ha hecho y hace una importante caja a cuenta de las administraciones públicas

del dinero público en nuestra opinión los servicios públicos han sido debilitados de manera consciente porque se buscaba un sector público débil y un sector privado que pudiera aprovechar los nichos de negocio en el ámbito de los servicios públicos

viviendo en exclusiva de estos por eso nosotras defendemos que junto a las necesarias políticas destinadas a revertir la situación

es también necesario empezar a revertir la política de externalizaciones practicada por este gobierno es tal la magnitud de esa política de externalizaciones del gobierno que llega incluso a los propios procesos de ope y se da el caso de que se contratan a empresas privadas

sobre todo en empresas públicas despilfarrando cientos de miles de euros en subcontratas a consultoras privadas cuando estos procesos deberían ser gestionados por los propios recursos humanos y función pública de la administración vasca

nosotros hemos dejado fuera de la transacción a la que hemos llegado con el grupo eh bildu a los que agradecemos su disposición a llegar a un acuerdo y también dejábamos de las propuestas que hemos hecho llegar a otros grupos a la hora de intentar negociar aun con el escaso margen de tiempo que teníamos la cuestión de las externalizaciones

para nuestro grupo es una cuestión muy importante pero que efectivamente a la hora de llegar a acuerdos sobre cuestiones más concretas nosotros no tenemos ningún problema en aparcarlas en debates concretos además de una iniciativa que lleva por nombre el tema

en el empleo público porque además el tema de la temporalidad de la interinidad pues como he dicho anteriormente es un problema además de muy grave pues en nuestra opinión ya en estos momentos urgente y sobre todo después

etcétera según el propio gobierno vasco no quiero ahondar demasiado en las cifras pero algunas me parece importante recordarlas en el día de hoy y sobre todo porque son cifras del propio gobierno vasco

últimamente como no puede ser de otra forma pues la interinidad es del cincuenta y ocho por ciento

en educación el cuarenta y cinco por ciento en educación la mitad de la plantilla prácticamente

realmente elevadas creo que eso nadie lo niega a estas alturas son decenas de miles de trabajadoras de trabajadores en una situación de temporalidad

públicos en euskadi son temporales prácticamente la mitad y las soluciones a estas cuestiones y ahí ponemos el foco en la iniciativa pensamos que el gobierno y ya se lo dijimos también a la consejera cuando interpelé

porque la desastrosa foto del empleo público que yo he intentado poner sobre la mesa hoy y que estoy seguro que no van a compartir los grupos que apoyan

es también consecuencia de la falta de capacidad e interés del gobierno vasco por la negociación colectiva con los sindicatos de la función pública que vienen denunciando esta situación desde hace años mientras la bola seguía engordando hoy como saben ustedes mientras debatimos se desarrolla

en todo el sector público vasco en todo el sector público de euskadi precisamente para luchar por la calidad en el empleo público es la primera huelga general yo no lo recordaba pero lo acabo de leer la primera huelga general en el sector público desde hace once años

a la mala situación del empleo público y para denunciar el modelo existente en euskadi incluida la reivindicación de poner fin a la política de privatizaciones y externalizaciones no solo denuncian la insuficiencia de ope que se hayan podido convocar en los últimos años denuncian también el fraude que se comete con los contratos

reivindican que se incrementen las relaciones de puestos de trabajo las plantillas estructurales y cuando plantean la necesidad de ampliar plantillas o de mejorar ratios

porque buscan disminuir las cargas de trabajo y regularlas en ámbitos donde ni siquiera están reguladas porque las plantillas en el sector público están asumiendo de manera generalizada cargas de trabajo insostenibles y lo estamos viendo ahora en

sabemos que no es la situación normal pero las cargas de trabajo denuncian los sindicatos

pensamos como decía que es absolutamente necesario por lo tanto activar en serio la negociación colectiva sabemos lo que nos van a decir los grupos que apoyan al gobierno porque hemos leído su enmienda y nos van a decir una vez más que el gobierno está negociando

para que se lo pregunten porque cada vez que pasan por esta casa nos dicen lo mismo no se está negociando a veces hay algunas reuniones a veces el gobierno nos informa

y que se negocie también la parte normativa de esa ley de cuerpos y escalas que ahora está sobre la mesa porque en la enmienda de

como decía una de las reivindicaciones que ponen encima de la mesa con la huelga de hoy una de las cosas que se están pidiendo que le están pidiendo al gobierno vasco es que negocie todas esas cuestiones su enmienda que tiene dos únicos puntos que finalmente han transaccionado con el

esos dos puntos pero incluyen una mención a los principios de mérito igualdad y capacidad a la que nosotros desde luego no nos oponemos

ni mucho menos hacen ese planteamiento en esos dos puntos no añaden nada más

es que lo único que se le pide al gobierno es que siga negociando cuando desde luego nosotros entendemos

negociando y por lo tanto ahí era difícil el margen de acuerdo nosotros planteamos que se negocie una hoja de ruta con su calendario

con su diagnóstico de la situación absolutamente necesario identificando las necesidades de plantilla de las administraciones públicas identificando las plazas planteamos que se elabore mediante esa negociación colectiva el plan para rejuvenecer una plantilla altamente envejecida

medidas de control y supervisión de la contratación pública porque a estas alturas ya nadie puede poner en duda que ha habido fraude y abuso en la contratación pública y las medidas

hasta la fecha evidentemente si existen han fallado por eso proponemos también esta cuestión que se negocien estas cuestiones en definitiva lo que proponemos

de un empleo público de calidad en euskadi para que euskadi tenga un sector y unos servicios públicos de calidad pensamos que es hora de que euskadi deje de ser medalla de oro en temporalidad y en subcontrataciones por ello proponemos que empecemos a negociar esa hoja de ruta o que empiecen a negociar gobierno y sindicatos esa hoja de ruta país deje de estar en el furgón de cola y se convierta en un país que sea reconocido por garantizar servicios y empleo público de calidad besterik ez

muchas gracias señora presidenta señorías miembros del gobierno y gracias al señor hernández por traer a la cámara pues una iniciativa sobre

también lo he compartido a veces con el señor hernández compartimos portavocía

el proyecto de ley sobre varios proyectos de ley uno de ellos sobre la cuestión relativa a la consolidación de empleo público es un debate de interés y yo creo

por supuesto pertinente el tema del empleo público podemos coincidir en alguna cuestión ahora lo mencionaré pero bueno

una que tiene que ver hombre con lo que es la negociación actual o el debate actual que tenemos en torno a la ley de cuerpos y escalas que

es la ley que a pesar del nombre quizá el artículo estrella como saben todos ustedes

o son dos disposiciones relativas a la consolidación del empleo público en euskadi

una de ellas que ha sido indirectamente declarada o considerada inconstitucional por parte del tribunal como y otra es

que propone hoy aquí el señor hernández a la que le reconozco interés aunque evidentemente nosotros

rebajado quizá un poco nuestras expectativas pero bueno consideramos que ha sido interesante llegar a un acuerdo

la señora larrauri para seguir avanzando en un problema que también nos atañe a todos

sí me gustaría hacer alguna consideración respecto a lo que es el empleo público en euskadi sí comparto parte del diagnóstico de que evidentemente la situación del empleo público en euskadi vamos yo creo que ningún grupo de hecho incluso la propia consejera

lo ha reconocido en la comisión y en este pleno la situación del empleo público en euskadi es una situación que necesita es mala y necesita la situación en la que está muchísimos empleados públicos necesita ser corregida

en algunos sectores es más del cincuenta por ciento una media del cincuenta por ciento puede ir reduciéndose pero en fin es una situación

y luego está lo que es la regulación en sí de la situación

esta situación en la que hay que aplicar casi medidas de cirugía que es en la situación actual buscar una solución para esta situación que tenemos

de empleo público para euskadi para la euskadi del siglo veintiuno y sobre todo para la ciudadanía en la comisión como saben todos ustedes señorías hemos recibido a todos los sindicatos creo que no ha faltado ni uno

que han dado todos su opinión en cuanto a la opinión de los sindicatos sobre las dos propuestas estas que había en la ley relativas a la consolidación

ha habido distintas opiniones como ya se sabe aquí hay sindicatos

la regulación general otros más pragmáticos dicen que sí pero bueno que habría que buscar esta vía de consolidación a través de unos procedimientos digámoslo así abreviados etcétera

y hay otra postura sindical como ya también se sabe que lo que aboga es por un tipo de consolidación que a lo mejor no pase por un concurso público pero que reconozca una situación digamos de hecho de acuerdo por alguna decisión interpretada también

de interpretación propio de la de alguna decisión del tribunal de justicia de la unión europea más o menos o las tres posturas que hay

a todos los grupos o durante el debate nos ha sorprendido precisamente esa decisión del tribunal constitucional a propósito por cierto de la ley de policía del país vasco que incluía una medida prácticamente similar o idéntica y que evidentemente

una de las dos medidas finales las dos disposiciones finales relativas a esta cuestión

la materia de empleo público evidentemente a mí personalmente y a nuestro grupo nos gustaría

algunos expertos nos han dicho que en materia de empleo público tenemos que ser más ambiciosos puedo estar bastante de acuerdo incluso yo sería más ambicioso que algunos de los expertos que han estado allí plantear reformas de mayor calado

la situación del empleado público que evidentemente también y tiene que ser una situación en la que haya por citar un concepto que hoy vuela sobrevuela este pleno que es la seguridad jurídica evidentemente y saber a qué atenerte pero también por otra parte de cara a lo que es el servicio que hay que prestar al ciudadano en españa vamos a tener un problema

cuando nos llegue la gestión de los proyectos y de los fondos europeos va a haber que subcontratar va a haber que contratar a través de la contratación pública un montón de expertos

muchas de estas cuestiones y aquí también se ha comentado y también es una cosa que forma parte del empleo público

en un tipo de empleo público más flexible no tanto en cuanto a lo que es el acceso etcétera también se podría hablar de eso sino sobre todo más flexible internamente en cuanto a buscar perfiles

pero bueno entendemos que es un problema el que hay la situación

muchos empleados públicos en situación de precariedad sobre todo en cuanto a las expectativas

pero bueno entendemos que es un problema que tampoco se soluciona de un día para otro y entendemos y por eso podemos rebajar o hemos decidido aquí

los grupos que apoyan al gobierno para avanzar un poco para avanzar un poco evidentemente claro la enmienda al final que hemos transaccionado la aportación que hemos hecho se refiere

la igualdad mérito y capacidad también yo presenté una enmienda inicialmente que hacía sobre todo hincapié en esto porque también

y lo consideramos importante añadir esto porque aunque evidentemente son principios que están dentro de la legislación

esta cuestión nosotros no me quiero extender mucho más en el debate sí que tenemos una preocupación importante con lo que debe ser el modelo

y de empleo público concretamente aquí en nuestra tierra en euskadi

en adoptar medidas primero para solucionar insisto este problema que es casi una operación

para acabar con esta situación y aquí nosotros también le hemos pedido al gobierno y lo hemos dicho muchas veces en comisión usted también lo sabe señor hernández que yo creo que es importante analizar las situaciones o

hay causas muy variadas y aquí tenemos también a veces incluso diversidad

pero hombre yo creo que es importante hacer un buen diagnóstico de la situación sobre todo para que esto no se vuelva a repetir porque aquí corremos el riesgo de que ahora vengamos más o menos se resuelva esto de la forma en la que al final salga y que de aquí a unos años volvamos a tener la misma situación esto es lo que yo creo

por eso digo que el reto es importante la ley de cuerpos y escalas se ha convertido prácticamente en la ley de consolidación del empleo público

y creo también que entre todos los grupos tenemos que hacer un esfuerzo para pensar cuál es el modelo y que le corresponde al gobierno llevar la iniciativa también de cuál es ese modelo que se quiere para el empleo público

y tiene que ser en mi opinión un empleo público que seleccione en virtud de los principios de mérito y capacidad y sobre todo que incluya una serie de medidas

esa flexibilidad interna que puede permitir el trabajar por proyectos y el cambiar de una función a otra como hacen

de otra serie de cuestiones que también son de interés nosotros seguiremos trabajando en la comisión de instituciones y gobernanza para mejorar las propuestas que se han planteado introduciremos enmiendas de interés espero poder persuadir por lo menos algunas enmiendas a los grupos del gobierno

para mejorar la administración que yo creo que se merece y que nos merecemos los ciudadanos de euskadi muchas gracias eskerrik asko gordillo jauna

lanean enpresa pribatuetan va a tener un momento siquiera

también mi compañero jon hernández en torno a las consecuencias intensas de la privatización de los servicios públicos de la destrucción del empleo público miren

estas son dos nóminas estas son dos nóminas no la verán desde sus escaños esta es una nómina del instituto foral

que percibe dos mil euros en su nómina esta en cambio es una nómina de una trabajadora de una residencia privada de una residencia privada

hace veinte años hace veinte años que se dejó de abrir plazas públicas en las residencias de araba

a que la atención se dé a través de residencias privadas cada vez que se toma una decisión así

para hacer el mismo trabajo desaparecen dos empleos públicos así dos empleos públicos así

esas son las consecuencias de la destrucción de

dijimos en este parlamento a la señora garamendi en nuestra interpelación de hace tres meses el conflicto de la interinidad

que el fraude y el abuso en la contratación laboral no es patrimonio exclusivo de la empresa privada e incluso parece compartir la misma cultura laboral en ocasiones hemos oído por parte del gobierno intentar justificar el abuso en la contratación temporal en la aplicación de las tasas de reposición impuestas por el gobierno del reino de españa pero las tasas de reposición solo vinieron a agravar una situación

por lo tanto la tasa de temporalidad del empleo público en la cav no es consecuencia solo

también es consecuencia de otras decisiones políticas que se han tomado aquí esto es son fruto de políticas concretas de este gobierno parafraseando al cesar de shakespeare la culpa querido bruto

sino en nuestros vicios baina tira

erabakiak como decía planteamos la negociación colectiva con los sindicatos como instrumento principal para abordar

vasco pero para ello para ello es indispensable es necesaria voluntad política y liderazgo y hasta la fecha no es esa la actitud y la aptitud que hemos encontrado por parte de este gobierno

hablar sin ningún tipo de veto sin ningún tipo de veto de al menos cuatro elementos uno el empleo interino y temporal en abuso y fraude de ley y plantear procesos extraordinarios de conciliación que tengan en cuenta y sirvan para resarcir las situación de precariedad

empleadas públicas en segundo lugar el empleo público temporal que por su

deba de calificarse como estructural pensamos nosotras y nosotros entre otras entre las miles de trabajadoras

y de una cadena de sucesivos contratos temporales en tercer lugar el empleo público necesario como consecuencia de la revisión de ratios y carga de trabajo y por último en cuarto lugar

como he dicho hasta la fecha no hemos constatado por parte del gobierno voluntad política en este sentido y la huelga también responde a la ausencia de esa voluntad política e interpela directamente a este gobierno por último hay una cuestión que ya ha salido en el debate tampoco sabemos cuál es la decisión del gobierno ante la reciente

constitucional que ha declarado inconstitucional una disposición de la ley de policía muy similar a la incluida en la ley de cuerpos y escalas que pretendía ser la que

por ello y a pesar de este revés no debe hacernos desistir en la apuesta por unos servicios públicos fuertes por unos servicios públicos fuertes basados en el empleo de calidad

y necesidades de nuestra sociedad exigiendo para ello al gobierno español que respete nuestro ámbito de decisión todo ello tal y como recogemos en el acuerdo firmado con los compañeros de elkarrekin podemos iu y que sometemos a consideración de esta cámara mila esker

señores consejeros señorías egun on guztioi bien pues dicen que la ocasión la pintan

señor hernández pero también dicen que la casualidad no existe y desde luego lo que no es casualidad de ninguna manera es que estemos aquí hoy pues debatiendo esta moción

es más yo creo que afirmaría sin temor a equivocarme que todos los presentes aquí hoy teníamos muy claro meridianamente claro que hoy veintidós de abril íbamos a estar debatiendo

cinco de marzo y que se presentó a su vez el mismo día en que se anunció por parte de la mayoría de una amplia mayoría de los sindicatos de

la convocatoria de la huelga en el sector público concretamente el uno de marzo

lo que tiene el relato de hechos y por qué estamos aquí hoy debatiendo esto no digo para que quede meridianamente claro que el tema no sea lo suficientemente importante como para traerlo a debate pero más allá de esa importancia intrínseca si estamos hablando de esto hoy que llevamos hablando de esto muchos días

comparecencias etcétera en iniciativas que se están debatiendo en este

es porque el proponente ha visto con toda la legitimidad

aprovechar un tema muy importante para plantear una moción que aparte de ser necesaria es una moción en este caso de oportunidad y realizada

efectivamente insisto en que esto es legítimo pero siendo un tema tan importante

necesario proceder a interponer o a presentar una moción

vayamos estudiando más si cabe lo que ya venimos estudiando en este parlamento con la consideración coincidente

de todos los grupos y digo que insisto

señor hernández yo creo que coincidimos todos creo que además el tono del debate está siendo absolutamente respetuoso porque coincidimos en realidad en el fondo en el núcleo

de previsión y está siendo objeto de previsión y acción por parte del gobierno

me remito quiero recordarles que el plan de gobierno que firmó firmaron firmamos el acuerdo de gobierno que firmamos los grupos que sustentamos al gobierno en este momento el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi

recoge expresamente acciones en este sentido concretamente incluye el compromiso ciento cuarenta y nueve cuya iniciativa primera determina la necesidad de aprobar una ley de empleo público vasco

según el calendario legislativo a finales de este año que reduzca las altas tasas de interinidad de la administración pública vasca y ello a través de procesos de consolidación del personal interino y de nuevas

que permitan efectivamente la renovación y el relevo generacional del personal público además se incluye también la iniciativa número dos en la que el acuerdo compromete al gobierno

de acceso a la función pública para hacerlos más transparentes ágiles cumpliendo de forma garantista los principios de igualdad mérito y capacidad

contenido en estas enmiendas que ya veremos cómo con qué resultado salen aprobadas de manera que

mentir que el gobierno tiene la voluntad y el compromiso de abordar estas cuestiones y que además lo está haciendo por otra parte

lo han dicho quienes me han precedido en el uso la palabra estamos tramitando en este momento en este parlamento digamos iniciando ya

de comparecencias en las que han desfilado por este parlamento todos y cada uno de los sindicatos amén de otra serie de

y en estos momentos como decía tenemos este proyecto de ley de cuerpos y escalas que como todos sabemos

y estructurar al personal empleado público con el objetivo de

eficaz y eficiente para responder a las necesidades de la ciudadanía vasca y que además prevé una serie de mecanismos

de reducir y disminuir de manera radical la alta temporalidad y como decía este proyecto se encuentra ahora en nuestras manos

significa que todos los grupos cada uno de los grupos parlamentarios de esta cámara puede hacer aportaciones puede presentar enmiendas puede introducir modificaciones que pueden llevar como resultado que se apruebe un texto que recoja en esencia el contenido de esta iniciativa que estamos debatiendo hoy e incluso de las enmiendas que podíamos haber presentado

también hay que aprovechar las oportunidades y es cierto que efectivamente hay muchas veces que queda mucho más visual más

presentar una serie de iniciativas necesarias insisto necesarias insisto creo que es consensuado este asunto

nos corresponde a nosotros también hacer un trabajo y un esfuerzo

hablaba el señor gordillo y también hablaba el señor rodríguez de la sentencia

constitucional en relación con la disposición transitoria de la ley siete barra dos mil diecinueve de quinta modificación de la ley de policía comparándola con las disposiciones adicionales que eran digamos el núcleo estrella de la ley de cuerpos y escalas y yo creo que esa comparación no es correcta

que traslado desde mi grupo parlamentario y que obviamente puede ser objeto

pero prever un pronunciamiento similar en relación a una ley y a una disposición que no es exactamente igual y además a una ley que

minusvalorar la labor que tenemos en este parlamento porque esta disposición adicional es la que viene en el proyecto y estamos aquí nosotros para intentar modificar o cuadrar las cosas para que no haya ningún problema de este tipo hablaba también no sé si el señor rodriguez o el señor gordillo de las sentencias recaídas en procedimientos interpuestos

en la contratación temporal y en fraude de ley hay muchas sentencias efectivamente en el país vasco hay sentencias que han dado la razón a los demandantes

en fin que podemos hablar de ellas muchas de ellas son discordantes

de justicia de la unión europea y en ese sentido por un lado tenemos

que reconoce efectivamente el carácter abusivo de la temporalidad

y que establece también que debe cumplirse el objetivo del acuerdo marco pero yo quiero recordarles otra sentencia mucho más reciente que es una sentencia de once de febrero de dos mil veintiuno que tiene un efecto positivo

de poder solucionar el problema de la estabilidad del personal público temporal víctima de abuso por vía legislativa porque parece ser insisto

víctimas de abusos en empleados públicos fijos o equivalentes a los fijos o de carrera dotándoles de estabilidad en el empleo ya que a tenor de la sentencia si un estado miembro no ha traspuesto la directiva mil novecientos noventa y nueve y no ha fijado una sanción efectiva y disuasoria para garantizar el cumplimiento de esta norma

se aplicará la ley que permita la conversión aunque esa ley fuera contraria a normas o disposiciones de carácter superior ahí lo dejo en cualquier caso es que

con su permiso presidenta le pido un minuto es que aquí coincidimos todos en que el abuso de la contratación es un hecho

por ello hay que buscar una solución definitiva

seguridad jurídica para dar respuesta a los empleados públicos que son en definitiva quienes están sufriendo esta situación respetando siempre esos principios que

de igualdad mérito y capacidad y también el derecho de la ciudadanía al acceso a la función pública así que en estos momentos

es la que de momento tiene en sus manos herramientas para

acotar la temporalidad

termino presidenta es iniciar ese camino yo les invito a recorrerlo tenemos mimbres existen mimbres y por lo tanto espero que ahí

el voto favorable para nuestra enmienda es usted muy amable presidenta eskerrik asko euzko abertzaleak larrauri andrea zurea da hitza

a la huelga y las aspiraciones legítimas de todos los trabajadores y trabajadoras a seguir mejorando sus condiciones laborales entendemos que es una huelga inoportuna precisamente en un momento en el que ha habido un especial reconocimiento público político y social

y las trabajadoras públicas en un momento de crisis económica y sanitaria en el que este sector no lo está pasando peor incluso que ha tenido ligeras

ligeras también en lo económico compartimos que hay cuestiones obviamente a mejorar como es la cuestión que abordamos hoy de la reducción de la temporalidad

a otros intereses sindicales y que desde luego

en el que hay importantes iniciativas en marcha y sobre las mesas

alcanzar procesos de consolidación eta mozioaren xedeari eutsiz

los grupos parlamentarios que defendemos al gobierno con el grupo popular vasco ciudadanos

acuerdo positivo en el que instamos a seguir trabajando para reducir esta temporalidad siempre dentro del marco jurídico vigente

mérito y capacidad no ha sido posible conseguir un acuerdo más amplio

como digo compartimos objetivo sin embargo la forma puede que difiera entendemos que no se puede hacer ver que partimos de cero hay un trabajo hecho y hay planes hay cosas sobre la mesa para seguir trabajando en ello

condicionar desde este parlamento hasta tal extremo la negociación colectiva las mesas lo que se vaya a desarrollar en las mesas de negociación

tiene que ser dentro del marco jurídico con seguridad jurídica sin generar falsas expectativas

a todos a todas se nos ocurren ideas pero no valen hemos sufrido hemos tenido recientemente nos han recordado a través de como consecuencia de un recurso del gobierno de españa

de la ley de policía vasca aprobada por este parlamento en dos mil diecinueve ámbito competencial que fue

esta ley en el parlamento incluso por los servicios jurídicos de la cámara cuando han defendido esa ley en el proceso constitucional en cualquier caso parece que el marco jurídico está claro y entonces bueno pues también

señor hernández que utilicen su influencia para fuera de lo que excede del ámbito competencial vasco

en cualquier caso siguiendo con el cómo entendemos que también debe ser con un diálogo abierto con negociación con todas las partes el gobierno vasco y el partido nacionalista vasco mantiene diálogo abierto en todos los ámbitos en los que está con voluntad de acuerdos en el político social técnico

las nuevas incorporaciones con el mantenimiento del conocimiento dentro de la organización es decir a través de procesos de consolidación sin crear agravios comparativos y teniendo mucho cuidado con los conflictos y agravios comparativos como digo o conflictos de intereses que se pueden dar

es muy heterogénea y se debe a diferentes causas no es lo mismo un interino que está en una vacante un interino que está en una plaza en la que tiene titular la casuística es múltiple con lo cual las soluciones deben también adecuarse las causas para haber llegado a las altas tasas de interinidad en la administración en general y en la vasca en particular

múltiples jubilaciones que ha habido en los últimos años con lo cual con las consiguientes

en sanidad en servicios sociales los fondos europeos múltiples necesidades que van surgiendo y que desde luego la administración no deja de contratar

se habla del debilitamiento de los servicios públicos para nada estamos de acuerdo hay un mantenimiento de servicios públicos

ni un debilitamiento de lo público y en cuanto a las externas como décimos las limitaciones que vienen del ámbito competencial especialmente

las tasas de reposición especialmente es verdad que están flexibilizadas pero

límites importantes para realizar procesos selectivos y han sido y suponen

el gobierno vasco no elude sus tareas sigue proactivo y dentro del marco que en cada momento tenga en ese momento el que tiene pues tiene importantes iniciativas sobre la mesa en este caso en primer lugar podemos hablar de la ley de cuerpos y escalas que bueno en este caso el gobierno vasco ya hizo sus deberes la tramitó aprobó el proyecto lo tramitó incluso con la negociación con la parte

ese proyecto de ley está en el parlamento vasco está en nuestras manos en las de los grupos parlamentarios veremos qué hace cada uno el señor rodríguez decía qué va a hacer el gobierno

directa como dice la señora gallástegui pero bueno parece que va a quedar afectada pues no es el gobierno somos nosotros los grupos parlamentarios los que tendremos que decir

hemos visto que ustedes han pedido una solicitud de prórroga para el plazo de enmiendas

veremos qué aportan y como digo

en este aspecto en cuanto al modelo también se prevén próximas iniciativas como es la ley de empleo público que seguro

en el modelo en sí del empleo público pero además sobre las mesas sectoriales están ya

importantes en todas las mesas sectoriales y

durante la presente legislatura tenemos claro por lo tanto gobierno vasco está en marcha dentro del ámbito vigente

ley de cuerpos y escalas ope negociación ordenar la casa organización de plantillas

y ha dicho claramente que corresponde a la normativa básica del estado

el régimen actual sobre consolidación por lo tanto es el estado señor hernández le insisto utilice también su influencia allí en el gobierno de españa en el que

nosotros gobierno vasco y partido nacionalista vasco como decía en todos los ámbitos ya estamos solicitando la modificación del ebep pero no una modificación que eso lo soluciona a futuro sino una modificación que

que mire también lo que hay hasta ahora porque en ese aspecto

está obsoleto que hable de consolidación y no solo de estabilización también hemos solicitado que

de las sentencias del tribunal de justicia de la unión europea como es

automáticamente de la relación temporal a fija o si deben surgir nuevas figuras jurídicas de funcionarios que entendemos que no

y qué consecuencias tiene el denominado abuso de la temporalidad que no está definido en qué consiste y por otro lado la eliminación de las tasas de reposición esas son nuestras reclamaciones

que ese compromiso realmente dé solución a estas cuestiones en cualquier caso como digo

en el marco que esté vigente en cada momento con el actual o si se modifica con el que se modifique exprimirá al máximo las posibilidades y

señor hernández que yo espero que solicite allí en todas partes con la misma exigencia a las cosas y utilice

bueno hoy el señor hernández nos trae un tema importante no cabe duda y además muy sensible compartimos el fin pero no los medios como no podía ser de otra forma como suele suceder cuando se debate este tipo de cuestiones los proponentes evitan el análisis en profundidad porque les quitaría parte de la razón sucede en otras administraciones pero en la pública vasca destaca por su enorme tamaño recuerdo un enorme jugador de fútbol americano del que todo el mundo quiere sacar ventaja y que se alimenta única y exclusivamente de comida vegana y pretendemos que funcione la administración vasca tiene un tamaño

aún más que todos los servicios externalizados vayan cayendo bajo el paraguas de lo público cada vez más cerca de cuba o de china a nadie sorprenderá si le cuento que vox defiende adelgazar la administración pública acabar con duplicidades como las que encarnan a la perfección las diputaciones forales reducir el número de municipios

también para reducir el ingente volumen de recursos que se dedican a financiar administraciones prescindibles y escasamente útiles

y termino además con otro enorme problema que condena a la eventualidad a miles y miles de trabajadores en nuestra región

y la imposición de condiciones que impiden el acceso de personas con magnífica cualificación a las administraciones públicas a un empleo estable en la administración pública

en la que se han invertido y malgastado ingentes cantidades de dinero desde hace al menos cuatro décadas los partidos en el gobierno insisten en exigir perfiles lingüísticos

para ser un buen médico enfermera bombero o administrativo es más importante el conocimiento en euskera que el de la función que se pretende desempeñar

notable de plazas con personal interino tan capacitado como el funcionariado pero que lamentablemente no tiene el pe ele dos de rigor esto es
lo que tenemos que decir al respecto gracias eskerrik asko martínez andrea

efectivamente señora gallástegui no es casual que traiga esta iniciativa coincidiendo con una huelga de las y los trabajadores públicos entiendo que no

engañarles y hacer creer que la traigo de coladillo efectivamente claro

coincidiendo con los planteamientos y las reivindicaciones que hacen los sindicatos los representantes de las y los trabajadores

desde luego respaldarles y nos parece que la mejor manera de respaldarles es traer nuestro planteamiento político a debate al pleno del parlamento vasco coincidiendo además con el día de la huelga en la que están

estas cuestiones esa es la razón sí

de la ley covid no de esto en el ámbito parlamentario

es que no es ninguna teatralización ustedes saben creo que son conscientes de que a mí no me gusta hacer teatro en el parlamento

importante es una cuestión que nos preocupa muchísimo es una cuestión de la que venimos hablando en el tiempo desde hace meses y que es realmente oportuno

elegidos a través de las elecciones políticas podamos debatir de una cosa que está en la calle de la mano de los representantes de quienes han sido elegidos en las elecciones sindicales

nos parece importante y sí algunas de estas cuestiones nosotros las vamos a discutir en el trámite de la ley de cuerpos y escalas que usted ha planteado

alguna otra portavoz ha planteado pero esa ley de cuerpos y escalas primero su objetivo

desde luego no es garantizar un empleo público de calidad en euskadi pero es que ni tan siquiera es resolver el problema de la alta temporalidad y eso lo hemos dicho nosotros y yo creo que más de un grupo lo ha compartido

puede ayudar a reducir algo los problemas de la altísima tasa de interinidad que tenemos en euskadi o a través de la disposición que en todo caso podría quedar pasando los filtros

es una iniciativa que recoge unas cuantas cosas que recoge unas cuantas cosas que no se van a resolver con esa ley de cuerpos y escalas

viendo cómo se trae la ley de empleo público no sé cuántas legislaturas yo desde luego no estaba aquí es la segunda que estoy y la ley de empleo público una de las primeras cosas que me encontré por parte de los sindicatos de la función pública cuando entré en este parlamento en la anterior legislatura y lo que nos decían

bien ustedes la van a traer ahora tienen mayoría absoluta veremos y ahí estaremos desde luego en ese debate pero a mí lo que más me llama la atención es que

bueno parezca que estamos todos más o menos de acuerdo coincidimos yo he hecho un diagnóstico entiendo que no lo compartan

necesito que me lo discutan pero de ese diagnóstico

ha compartido sobre el modelo sobre el origen del modelo es de donde parten las iniciativas

que ponemos encima de la mesa de ese diagnóstico y una parte fundamental de ese diagnóstico pues a la que

que más allá de la enumeración de motivos que nos han llevado a esta situación que la señora larrauri ha hecho una enumeración de muchos de ellos detrás de ellos detrás de ellos en nuestra opinión hay una motivación política hay un modelo hay un modelo político nosotros pensamos

el que ha dicho es importante analizar las causas y luego parecía que estábamos de acuerdo yo he analizado las causas estoy seguro que usted no está de acuerdo con el origen de las causas

que yo he planteado ahora si vamos a estar de acuerdo en las soluciones

es que se negocie con los sindicatos la señora larrauri

el diálogo pues su iniciativa no dice que siga manteniendo el diálogo

nos llaman a veces nos llaman cuando les llamamos mucho nos llaman a veces nos sentamos

eso es lo que nos dicen los sindicatos y eso es lo que les pedimos nosotros en esta iniciativa

y con cuestiones concretas y una última referencia nos pide la señora larrauri que utilicemos nuestra influencia en españa sobre todo para alguna de las cuestiones modificación del ebep entiendo

nos van a encontrar y desde luego que lo vamos a hacer y siempre lo hemos venido haciendo pero hace unos años

para que este parlamento rechazase unos presupuestos generales del estado impulsados por el partido popular y una de las cosas que decía es que ahí se estaban incluyendo esas tasas de reposición las más duras las que impulsó montoro además condicionadas a otras cuestiones

un debate de españa y que lo hacía para perjudicar al pnv porque estaban dando respaldo ustedes a esos presupuestos

se olvidan que eso ustedes están apoyando esa agenda vasca y con esto solamente quiero decirle que desde luego si vamos a empujar en esa dirección nos encontraremos
pero nosotros tenemos dudas sobre todo porque el gobierno este gobierno donde han estado ustedes amaitzen joan sí termino ya señora presidenta

durante la mayor parte del tiempo pensamos que impuso un modelo concreto un modelo concreto que nosotros cuestionamos que ha dado como resultado esta altísima temporalidad que en euskadi es mayor que en otros sitios pero también ese modelo de externalizaciones

de perjudicar al empleo y a los servicios públicos eskerrik asko hernández jauna euskal talde popular ciudadanos taldeko ez du hitzik hartu behar

yo creo que entra casi dentro del campo razonable que cuando los empleados públicos

debata en torno a sus reivindicaciones segundo elemento inoportunidad de la huelga la huelga para este gobierno siempre es inoportuna siempre en cualquier caso en cualquier contexto es inoportuna nos podrán explicar de una vez

que una huelga es oportuna sobre

es cierto es cierto que irrumpe las tasas de

preexistente porque al analizar las causas que muchas veces les escucho

sobre el diálogo bien el diálogo se define

dos o más personas que alternativamente manifiestan sus ideas o afectos el problema es que ustedes se han saltado esa primera acepción y han ido a la segunda acepción de diálogo

en que se finge una plática o controversia entre dos personas se finge insisto plática o controversia entre dos o más personas

más claridad al respecto de lo que pretenden hacer porque tienen mayoría absoluta

no sabemos qué pasará con la ley de cuerpos y escalas me ha parecido esto

eztabaidatik desbideratzeko ha llegado el momento de decir adiós porque al punto de esta intervención no le quedarán dos puntos suspensivos ia hiru urtez borrokatu ondoren orain dela aste batzuk nire

ditut para hacerle al mundo mejoras y para volar

únicamente tiempo del tiempo perdido en causas perdidas nunca me he arrepentido ni estando vencido cansado o prohibido

queriendo no equivocarme en nada por cierto fallé alguna jugada y tal vez te extrañe no me arrepiento tal vez de nada

a mis compañeras y compañeros a quienes se sientan aquí

a quienes desde la discreción me han acompañado en el día a día mila esker

a todas y a todos buenas noches y buena suerte

es decir no tenía una lectura digamos distinta lo que sí sé

doy por hecho que lo hace por la huelga no ha hecho una moción en relación al apoyo del grupo parlamentario elkarrekin podemos

al sector en huelga pero en cualquier caso lo que le digo es simplemente que era un comentario en relación a esta cuestión y efectivamente hacer una moción específica el día de huelga en relación con un problema que se está tratando y que se está debatiendo una parte de teatralidad o no yo considero que sí y por eso así se lo he trasladado pero esa es otra cuestión

en alguna cuestión que ha hecho usted respecto de la necesidad de hacer una valoración de por qué hemos llegado hasta aquí pues efectivamente por muchas causas

y en lo que se ha acordado en lo que se ha acordado en un acuerdo de gobierno que se firmó como digo y que da lugar a que en este momento dos grupos de este parlamento el partido socialista de euskadi y el partido nacionalista vasco

a la que en este momento se ha adherido el grupo popular

mención que me gustaría señalar una cosa decir simplemente señor

en que si hacemos un análisis de las causas probablemente el resultado de ese análisis sea distinto

para cada uno de los grupos pero lo cierto es que hay una situación de hecho que es la que es y en la que coincidimos todos y a la que estamos en visos de poner

relativo a que la normativa básica pues

yo comparto yo creo que efectivamente el gobierno vasco tenemos muchos mecanismos en euskadi tenemos muchos mecanismos para poder atajar

de poder hacerlo y de hecho yo creo que la señora larrauri ya lo ha dicho en realidad cuando ha intervenido aquí en el primer turno

en esta cámara tienen representación en el congreso de los diputados y sabrán por ejemplo que en octubre del dos mil veinte se planteó desde el grupo socialista en sede de la comisión de administración pública una iniciativa parlamentaria en orden a hacer una modificación del estatuto vasco del empleo público porque como ustedes saben aunque esta ley que se aprobó en el dos mil siete supuso un logro importante de desarrollo además constitucional para modernizar

normativa y además fijó también un modelo de función pública

un marco porque esto lo dice esta ley de relaciones laborales para la negociación colectiva cuando luego se hace ese real decreto que digamos establece el texto refundido de lo que es la normativa en ese sentido se incorporan un montón de cuestiones que han venido aprobándose a lo largo de este tiempo

seis años pues toca reformar muchas cosas y por eso también

diciembre concretamente creo que es el último día del periodo de sesiones del último periodo de sesiones del año dos mil veinte creo que el treinta de diciembre hay un amplio acuerdo mayoritario en el que por cierto no está el partido popular no está bildu en relación a la necesidad de

cómo votantes a favor de esta iniciativa en la que se plantea por todo el resto del arco parlamentario muy amplio por cierto

que se proceda a una reforma a una modificación del estatuto básico del empleado público con

teniendo en cuenta a las centrales y representación sindical y con el objetivo principal de disminuir y constreñir y eliminar en su caso progresivamente

en ello estamos entiendo que además en este parlamento cuando lleguen estas leyes que también tendrán me estoy refiriendo a la ley de empleo público estoy segura que con estos mimbres
pues podremos llegar a un acuerdo amplísimo o por lo menos suficiente para poder mejorar las cosas gracias eskerrik asko

al gobierno nunca le parece oportuno el comentario era como grupo parlamentario en relación a los cuerpos y

han solicitado una prórroga en la fase de enmiendas y no sé si el misterio será que no han tenido tiempo de momento para mirarlo espero que le dediquen tiempo y

aporten buenas propuestas y en cuanto a la exigencia aquí ustedes son muy exigentes son muy exigentes pidiendo al gobierno vasco que haga sus deberes no se preocupen que el gobierno vasco está en ello pero también le pido que sean tan exigentes en todos los foros aquí y en madrid

tan exigentes en madrid y les vemos bastante amen amen que igual es lo que tiene que ser pero bueno que

coherentes y consecuentes y en lo personal le deseo lo mejor en su nueva

y señor hernández bueno pues lo sobre las externalizaciones que antes no

hay un fortalecimiento como decía de los servicios públicos

eso no quiere decir que en ciertos momentos haya una colaboración público privada pero desde luego hay un respeto a los derechos laborales y cuando se habla de reversión los

no hablan de reversión hablan de a futuro entonces bueno pues también intentemos desde aquí desde el parlamento modificar esos acuerdos sindicales

del sector público y el sector privado pues precisamente en este momento es bastante

privado lo está pasando bastante mal y efectivamente la temporalidad en el sector privado ha descendido en parte y como digo lamentablemente pues debido a eso ere y a esos erte que no sufre el sector público

bueno pues no partimos de cero insisto no partimos de cero el gobierno vasco no va a eludir su responsabilidad sus tareas en el marco vigente va a seguir con las ope

pero bueno si hay una posibilidad de una mejora del marco jurídico

y no tenga ninguna duda que defendemos la eliminación de las tasas de reposición porque es público y notorio

así pusimos de manifiesto todos los lugares en los que hemos participado y sin más esperemos que entre todos en lo sucesivo pues podamos llegar a acuerdos

para mejorar la situación en lo que nos corresponde el ámbito parlamentario para mejorar la situación del empleo público besterik gabe

la naval ontziolaren inguruan la naval ontziola

una frase que es quizás un poco ñoña que es más propia de calendarios con payasetes o con el sol saliendo entre las nubes pero que bueno no deja de tener su gracia y que dice aquello de que si lloras

y es verdad que en estos momentos las lágrimas y la tristeza que nos produce la desaparición de un astillero histórico como el de la naval

desde la responsabilidad en aportar soluciones que en cobrarse facturas la navalen amaiera suposatu dezake espero dezagun eta horretara gatoz

muera de inanición como hemos dicho en otras ocasiones pero es más triste aún que la empresa muera de indigestión tenía cartera de pedidos estaba trabajando y tenía garantizado a medio y largo plazo también que iban a nuevos pedidos hor azpimarratu behar da

en un momento de los múltiples debates que hemos tenido con esta cuestión sobre todo en la pasada legislatura reprochaba al gobierno vasco su pasividad y traía a colación una obra del teatro de lo absurdo esperando a godot y el gobierno vasco esperando y esperando

un colaborador con su actitud pasiva de este desgraciado cierre el gobierno vasco ni rescató a la naval

ni construyó una alianza público privada que podría haber dado continuidad a la actividad del astillero

en la situación en la que nos encontramos aukera guztiei la naval salbatzeko aukera guztiei bizkarra eman ondoren gertatu da

en algunos momentos se ha reprochado la actitud de los trabajadores en concreto el recurso contra los despidos acusándoles de ser los que han obstaculizado la llegada más temprana de un inversor que pudiera haber dado una continuidad a la actividad del astillero creemos que eso es una excusa una simple excusa

de los acontecimientos porque ha habido tiempo de sobra para primero negociar con los trabajadores la retirada de ese recurso si realmente había algún interés por parte de algún inversor e incluso una vez que el recurso fue desestimado por el tribunal supremo para haber presentado una oferta a tiempo antes de la última fase de la liquidación

nosotros lo que creemos es que las empresas interesadas que ya estaban allí ponían o han puesto la excusa de que había un recurso en marcha

de comprar a precio de saldo los astilleros y les ha salido mal ha sido un error de cálculo creo de las empresas y del gobierno vasco esperar tanto

que sí ha sabido valorar el gigantesco potencial que tienen esos terrenos y ha hecho una oferta mejor eta horrela gaude orain gauden egoeratan enpresa logistiko batek

del lugar pero entendemos que es posible que si existen ofertas interesantes del ámbito industrial a este casero

le puede llegar a dar igual hacer almacenes hacer centros logísticos o

puede maximizar su inmersión porque todos sabemos que las empresas industriales generalmente

mediante su producción de valor añadido también pueden generar mayores beneficios por tanto nos queda un trabajo

en la buena dirección animar a las empresas industriales a que no desistan a que hagan sus ofertas animar al nuevo dueño de los terrenos a que sea sensible a esa realidad y como decía más aún teniendo en cuenta que la legalidad urbanística impone unos usos

y partiendo de nuestra memoria industrial debemos ser capaces también de recuperar e intensificar

de esta comarca y esto se enlaza con la última de las cuestiones veo que se me acaba el tiempo de forma telegráfica pero también como suele decirse no por ser la última es la menos importante

industriales en la margen izquierda que defina las características de esos suelos de esos terrenos y que permita su puesta en valor y su utilización para la atracción de inversiones de carácter

recontar lo que tenemos sino que se trata de activar una dinámica de puesta en valor que permita atraer mejores

de transición energética del coche eléctrico de un montón de cuestiones que tienen su derivada

nos van a exigir levantar un poco el pie del acelerador de la producción y del consumo también es evidente

suelos disponibles en una comarca que necesita de ese tipo de inversiones como la margen izquierda para poder alojar

alineen con esta cuestión y una última y muy breve cuestión

que gana tanto el grupo proponente como los grupos que la han apoyado y especialmente los que sustentan al gobierno pero que sobre todo gana el conjunto de la sociedad yo no creo que hoy el gobierno salga perdiendo en absoluto al contrario creo que sale fortalecido y no creo que el gobierno

absoluta de la que tenía ayer al contrario creo que ha sabido aprovechar y ser generoso aprovechar las sugerencias de otros grupos también defender sus planteamientos integrarlo todo en una propuesta que como decía es una propuesta en la que todos y todas salimos ganando pero sobre todo sale ganando la sociedad

egun on buenos días a todos y a todas efectivamente como decía el señor casanova la verdad es que estamos ante un hecho no sé si decir

inédito pero sí desde luego bastante sorprendente respecto al acuerdo que

de esta cámara básicamente porque va a ser el único y ya probablemente último acuerdo posible en relación con lo que ha sido un absoluto

es decir el cierre de la naval escuchaba el otro día en la radio a la periodista y escritora

hablando del sentir respecto a su comarca que siempre

la crisis una generación en lucha defendiendo siempre su puesto de trabajo luchando por la sostenibilidad en definitiva

de su valle de su pueblo y lo mismo se podría replicar o se podría decir de otros tantos lugares de nuestro país y el de la naval es un ejemplo paradigmático

y la falta de apuesta del gobierno vasco en este sentido por la defensa de lo que tiene que ver con lo que en un momento dado fue algo muy característico del desarrollo económico de nuestro país que era

por desgracia por lo menos en lo que respecta a la apuesta del gobierno vasco en este sentido

aminorándose porque claro sí que es cierto que tenemos motivos para congratularnos respecto a este acuerdo pero también es cierto que como bien se ha dicho

ya del proceso y hubiese sido desde luego mucho más provechoso haber alcanzado un acuerdo previo que no hubiese supuesto

trabajadores y trabajadoras se hubiesen tenido que ir a la calle un astillero que hace tres décadas disponía de

disponía también de un valor añadido indirecto en la comarca es decir que además de los trabajadores y trabajadoras directamente empleados también

de crecimiento y de empleabilidad en el entorno y por desgracia ya decía que esto ha sido por la falta de apuesta del gobierno vasco en relación con

de algo tan simbólico y tan importante como era la naval en cambio en otros lugares de nuestro entorno

rescataba a los astilleros con un rescate de más de cuatrocientos millónes el gobierno escocés también nacionalizaba

constructor de ferris y qué decir de china que se ha configurado como el mayor constructor de buques del mundo con la fusión de dos empresas estatales hubiese habido fórmulas por parte del gobierno vasco para no haber llegado

pero la realidad es que estamos donde estamos y desde luego sí que creemos que es una buena noticia que por lo menos el sentir de todos los grupos

ser esos suelos tal y como figura en la normativa además que califica el suelo vaya dirigido a actividad aunque ya no pueda ser la que hasta ahora era el motor

los acuerdos que se han adoptado en relación con lo que tiene que ver con el inventario patrimonial porque creemos que el que se presentó por parte del viceconsejero de cultura era francamente insuficiente

incidir mucho más en esta cuestión porque efectivamente sería hacer un cierto

metálicas son muy relevantes para generar también un valor añadido en términos económicos a lo que fue

tenemos y no figura así en el inventario realizado hasta la fecha por parte del gobierno vasco la estructura metálica más antigua que se conserva en el estado

nave de todo el estado enteramente conformada por una estructura metálica

de cultura así que nos parece fundamental que en este caso se revise y se vuelva a definir un nuevo inventario patrimonial que enriquezca

de lo que queda de la naval

en este sentido el acuerdo adoptado también es una asunción por parte de los grupos que sostienen al gobierno de la necesidad de

de la necesidad de revisar lo que hasta ahora creemos que está siendo una estrategia absolutamente fallida en lo que respecta

mencionado más de una vez en esta cámara básicamente se basa en generar un ecosistema básicamente una pista de aterrizaje en términos

fondos de inversión que nada tienen de arraigo y no tienen ningún interés por las condiciones de vida de la ciudadanía y más allá de eso la generación de startups que no conducen prácticamente a nada porque

la generación de investigación y desarrollo de calidad liderado desde lo público en este caso no es decir que el ecosistema que se pretende generar en términos industriales y de desarrollo económico parte de un diseño erróneo que no genera las condiciones necesarias para que aquí se produzca una transformación y una reconversión de lo que hasta hace unas décadas

es verdad que ha habido sectores que han tenido que cerrar por falta de

la naval tenía perfecta capacidad de mantener la producción porque existía demanda y el hecho de que no se haya querido mantener esta actividad no sabemos exactamente a qué se corresponde más allá de la renuncia del gobierno vasco a seguir potenciando actividad nos preocupa sí que la condicionalidad del primer punto respecto

vaya hilada a lo que la consejera arantxa tapia alguna vez ha comentado respecto a lo que para ella

mandato espera que alcancemos un cuarenta por ciento elevemos la actividad industrial en este país a un cuarenta por ciento pero claro siempre diciendo que

esta elevación al cuarenta por ciento tiene que ver con todas las actividades conexas a la actividad industrial no termina de definir exactamente qué es entonces tenemos dudas respecto a lo que pueda terminar siendo la actividad que se instale en esos suelos en cualquier caso ya digo nos parece una buena noticia que por fin hayamos tenido oportunidad de sumarnos las diferentes fuerzas políticas de esta cámara o la mayoría de ellas para adoptar un acuerdo común en relación con esta cuestión aunque ya digo venga tarde y esperamos que a la vista de los procesos

de desindustrialización y de cierre progresivo de ciertas empresas y de procesos de ere que se están dando en ciertas empresas de nuestro país

estertor del momento de la agonía sino que se produzcan previo al momento ya en el que no queda nada por hacer

los suelos y la elaboración de los inventarios de la maquinaria sino que creemos que en

francamente mal que desde luego el gobierno vasco adopte liderazgo en este sentido y que también los grupos parlamentarios que sostienen al gobierno

en estos casos también se presten al acuerdo y a la colaboración

la capacidad de acuerdo que muchas veces se dice respecto a los grupos parlamentarios de la oposición que somos del no por el no y a la vista está

también haya cierta voluntad por parte de los grupos parlamentarios que sostienen al gobierno a la hora de moverse que por lo general

muchas gracias señora presidenta bueno nosotros pensamos que para

dentro de la situación general de la margen izquierda la margen izquierda como creo que todos compartimos es una de las comarcas más castigadas por el desempleo y por la falta de oportunidades

referidos a sestao como por ejemplo digo a sestao que nos puede servir como análisis perfectamente extensible a multitud de municipios de la comarca no la tasa de paro

a la media de euskadi y es el segundo municipio de euskadi con la tasa de paro más alta por cierto el primero es oyón

en el ochenta y uno sestao contaba con treinta y nueve mil habitantes casi cuarenta mil en el dos mil dieciocho su población se ha reducido un treinta y dos por ciento

de sestao en dos mil dieciocho equivale al cincuenta y siete por ciento de euskadi desde dos mil ocho

pero es que en mil novecientos noventa y seis la industria suponía el cuarenta por ciento de valor añadido bruto en sestao y ahora no llega ni al diecisiete por ciento

una foto de la situación actual que muestra cómo la margen izquierda

ochenta cuando un municipio pierde uno de cada tres habitantes en las últimas décadas se debe principalmente al abandono de responsabilidades de la administración pública

no quiero decir que no se hayan puesto en marcha planes de reactivación o reindustrialización

lo que sí que puedo decir lo que sí que digo es que los planes que ha implementado el gobierno no han sido efectivos

entiendo que la moción inicial de bildu no era o tenía la intención fundamental

y carentes de cualquier tipo de propuesta realista para promover la industrialización de la comarca había acusaciones un tanto genéricas de lo que se podía haber hecho

invierte treinta y seis millónes de euros en una de las comarcas más desfavorecidas de euskadi

saben ustedes cuándo fue la última vez que una empresa privada invirtió treinta y seis millónes de euros en sestao como decía están en su derecho de

pero atacar a los pocos inversores que tenemos no creemos que sea defender euskadi la transacción a la que

no nos parece mal y tengo que decirles que en consecuencia no vamos a votarla en contra

nuestra enmienda incluye una propuesta mucho más ambiciosa y por ello la mantenemos

claro que nos gustaría a todos creo que este tema se hubiera gestionado de una manera diferente

acaba en concurso de acreedores es una pérdida es un fracaso para todo euskadi sin ninguna duda claro tampoco cómo interpretar bien alguno de los párrafos que aparecían en la propuesta inicial de bildu se estaba pidiendo que el gobierno vasco interviniese de alguna manera en un proceso judicial de liquidación espero

porque eso sería grave ilegal y un poquito antidemocrático así que

nuestra propuesta nuestra propuesta que como les digo va dirigida sobre todo

a la margen izquierda primero modernización y adaptación de la red de polígonos industriales que creemos que es uno de los mayores activos que tiene la margen izquierda en el dos mil veinte como ustedes saben había una partida dotada con dos millónes de euros que le llamamos el plan renove

esa partida por alguna razón se ha reducido un setenta y cinco por ciento creemos que hay que invertir más en los polígonos industriales que tenemos son infraestructuras

para realizar su actividad pueden ser un factor importante de competitividad y ayudarnos a incrementar el peso de la industria esta iniciativa

y fue rechazada por el gobierno como todas las demás de toda la oposición segunda propuesta un plan de formación y recapacitación para que los niveles de empleo converjan con los del resto del territorio

los astilleros contaban con una red de proveedores en la zona de más de quinientos empresas

la misma preocupación se cierne sobre los puestos de trabajo inducidos e indirectos y precisamente por eso pedimos en nuestra enmienda a la totalidad

para la margen izquierda con especial incidencia en los parados mayores de cuarenta y cinco años con los que por cierto tenemos una especie de estigma pensamos que tienen dificultades por su edad

en desterrar formación formación y formación

en esta tribuna muchas veces porque soy un defensor casi profesional de la formación continua en el mercado de trabajo

en nuestro activo más importante que son las personas la competitividad se multiplica y esto como administración pública tampoco se ha hecho especialmente bien tercera propuesta concreta

que incentive inversiones industriales que defina objetivos pero objetivos medibles para poder hacer un seguimiento y asegurar su cumplimiento en el dos mil dieciocho ya se

pero está claro a la vista de la situación actual que su desempeño no fue muy relevante por eso quiero poner el foco en que en esta ocasión se pongan objetivos concretos objetivos

necesitamos un nuevo plan de choque para la margen izquierda para el periodo veintiuno veinticuatro

es necesario ayudar a los negocios que dependían de la naval en la comarca que además es una de las más afectadas por el desempleo en euskadi y cuarta propuesta luchar contra la despoblación despoblación perdón de la comarca

que quieran emanciparse y no tengan que irse a otros municipios a hacerlo en fin se pueden implementar otras muchas iniciativas y en ese sentido desde aquí le tiendo la mano

para que si lo desean nos sentemos a definir una hoja de ruta para la margen izquierda hablar hoy

pero no debemos olvidar que el problema no es solamente este astillero que está en una zona con mucho problema

escuchando la interpelación sobre este asunto que se produjo el día veintiséis de marzo y la moción que ahora debatimos me surge una inquietud

pero en este caso consideramos que un proyecto empresarial privado fracase

pero el gobierno vasco sí es responsable de ofrecer alternativas a la comarca planes de empleo

al ser una comarca especialmente desfavorecida y no lo está haciendo

tienen el objetivo de conseguir por lo tanto esta convergencia económica de la comarca con el resto de euskadi

por último como digo mano tendida al gobierno para buscar soluciones

u otras hay muchas que se pueden poner encima de la mesa desde nuestro grupo estamos dispuestos a trabajar y a remar a favor pero si el objetivo que pretenden

bermatzeko el astillero la naval indudablemente

los buques pasaban por debajo del puente colgante camino de la mar abierta buques embarcaciones que han sido un emblema de euskadi toda una seña de identidad que por desgracia

del pasado pero como todo lo malo hay que intentar sacar virtud e intentar revertir una situación que desde luego a los socialistas vascos nos preocupa más allá de lo simbólico de lo nostálgico o de lo que en un pasado pudo representar un emblema

un nuevo tiempo una nueva oportunidad está llamando a la puerta una ocasión para impulsar la actividad económica para revitalizar la margen izquierda y generar empleo en una zona especialmente

los socialistas no abogamos por la desindustrialización sino por favorecer

que ha sido una de las enseñas económicas de dicha margen según lo establecido por la normativa urbanística al menos el cincuenta y uno por ciento de los terrenos de la naval

la garantía que debe prevalecer para el mantenimiento futuro de la actividad

en este sentido y en lo que respecta a la participación de los socialistas vascos en todas las instituciones desde los ayuntamientos bien el gobierno algunos de ellos liderándolo

como en los gobiernos de coalición tanto en la diputación foral como en el gobierno vasco mantenemos nuestro compromiso

lo establecido en la normativa los socialistas vascos cerramos la puerta a cualquier movimiento especulativo en este sentido tenemos que ser garantistas y hacer valer

es el aval para que la actividad económica tenga una puerta abierta al futuro la enmienda transaccional que hemos firmado

creo que es una gran noticia más allá de lo que pueda suponer el hecho de que una inmensa mayoría de este parlamento haya llegado a un acuerdo primero porque consideramos que un acuerdo en esta materia sienta las bases de lo que la mayoría

en el que se podían haber abierto diferentes posibilidades es un punto en común que nos permite

en diferentes aspectos importantes todos ellos los reflejados en esta enmienda transaccional para garantizar un buen futuro a estos terrenos en primer lugar en el ámbito estrictamente institucional entendemos que todas las instituciones deben facilitar y promover apoyar en definitiva

a sus competencias fórmulas que maximicen la generación de empleo y valor añadido de carácter industrial en consonancia con la calificación urbanística de los terrenos de la naval en segundo lugar porque en dichos terrenos se encuentra parte de la historia industrial de la historia en definitiva de euskadi hay un patrimonio conformado por grúas instalaciones que representan desde luego un valor

más representativos con mayor valor que sirvan a las generaciones futuras como elementos de conocimiento de su pasado y que les sirvan también como aprendizaje y como base para seguir manteniéndolos en un futuro por ello y al amparo de la ley de patrimonio debe ponerse en marcha el procedimiento necesario para su conservación

la garantía de conservación de una parte importante de nuestra propia identidad como país y por último y al fin de facilitar una planificación destinada a atraer

entendemos también que era imprescindible elaborar un inventario de suelos industriales en el que se recoja la dimensión de los terrenos su situación la propiedad nivel de ocupación y otros datos de interés para que precisamente esa planificación esté ajustada esté bien orientada para garantizar un buen

futuro económico garantizar puestos de empleo estables y de calidad en esas

importantes bajo nuestro punto de vista que deben ser a su vez

realidad un futuro en definitiva que traiga riqueza como decía en forma de empleo estable y de calidad que a buen seguro es la mejor garantía

en esta cuestión una oportunidad de progreso y de modernidad eskerrik asko eskerrik asko andueza jauna euzko abertzaleak

proceso en un concurso de acreedores y según la ley el objetivo primero del concurso de acreedores es resarcir una deuda

a cuatrocientos cuatro proveedores por tanto yo quiero recordar que hay cuatrocientos cuatro familias

balances contables cien millónes de euros de pérdida y que no tiene ningún altavoz en ningún sitio no tienen sindicatos no tienen ningún representante y hoy aquí quiero iniciar mi intervención recordándoles

años con esos gigantescos socavones en sus cuentas de resultados

por tanto legalmente el primer objetivo del concurso de acreedores es resarcir

y es por ello que la señora tapia no puede levantar el teléfono o el alcalde de sestao no puede levantar el teléfono

la tercera puja que la primera o me gustaría que entre la segunda y la cuarta hicieran ustedes

fuera el idóneo porque esos treinta y seis millónes de euros que ofrece la empresa belga no son de la señora tapia no son míos no son del señor casanova o del señor soto son de todos los contribuyentes vascos y

que verán resarcido en solamente una tercera parte esos enormes socavones económicos lo que pasa que aquí confluye un segundo interés y que es un interés de país que es

el mejor aprovechamiento a unas tierras lo ha comentado el señor casanova que están en una ubicación ideal al lado del mar además un mar con cierto calado tienen rampas catorce grúas activas y por tanto hay un segundo interés principal que es el de traer a esas instalaciones el posibilitar que en esas instalaciones exista una actividad industrial que genere valor añadido que genere riqueza

que genere empleo y en ese interés de pueblo que tenemos los vascos

descansa sobre la exigencia del plan general de ordenación urbana de sestao que establece

por tanto tenemos por un lado a una jueza que está llevando a cabo el concurso cuyo objetivo principal es resarcir la gigantesca deuda que deja la naval y por otro lado

está en estos momentos en proceso de hacer un nuevo

esta última semana además de una forma muy apasionada que no van a cambiar el uso de los terrenos por tanto

para garantizar que en esa tierra haya un uso razonable que genere valor añadido y a la vez resarcir

ahalik eta altuena hori nik uste dut denok ikusten dugula por tanto estamos en este momento hay que dejar que la jueza termine el concurso de acreedores y ver

la empresa belga que es la que más ha pujado pero bueno una vez se fije el orden de pujas

desde luego es intención del gobierno poner en común poner en contacto a esas empresas para buscar la fórmula

permítame en este ambiente de fair play incluir alguna pildorita de crítica además lo hago en el primer turno para que me puedan contestar pero yo aquí en esto de

qué partido está en el gobierno porque dependiendo de cuál sea hay proyectos industriales que no van a salir nunca

de escaqueo político la primera es la participación sobre la cual hay partidos en este país

que se escudan que se parapetan detrás de la participación cuando no quieren decidir o cuando tienen mucho debate interno y la segunda

son las interpretaciones torticeras de la ley por ejemplo de los planes generales de ordenación urbana

nosotros aquí no nos vamos a escaquear hay un pgu nuevo en marcha pero no va a haber ninguna modificación tal y como

al inicialmente establecido y que las empresas que han pujado conocen de antemano

un discurso un poco general de la margen izquierda mire la pasada legislatura usted lo sabrá creo que lo ha mencionado hubo una ponencia para la reactivación de la margen izquierda

hay un plan plurianual de actuaciones y es ahí donde tenemos que poner la fuerza no en hacer un segundo plan de choque

en normar en estructurar ese plan plurianual

otro instrumento lo que está hecho desde la legislatura pasada es un esquema válido para el futuro señor soto hablemos de modelo porque usted y lo hace en todos los ámbitos podemos no educación suecia no sé condiciones laborales

menciona escocia y dice usted el gobierno escocés nacionalizó un astillero

que es un caso todavía peor y más palmario pero el caso escocés

nacionaliza porque al finalizar el concurso de acreedores no hay ninguna puja y por tanto es una situación de transición que no se va a alargar en el tiempo

menciona china mire en euskadi tenemos

que han encontrado un nicho un nicho de mercado que es el de barcos medianos relacionados sobre todo con

que son rentables sobre todo porque los tres tigres asiáticos que son en el ámbito naval japón corea del sur y china

pero desde luego no vamos a volver a ese modelo desarrollista que tenía euskadi que tenía también el estado español hace

la primera es el coste laboral bajo la primera es el coste laboral bajo

la hora de trabajo similar o incluso superior a la de euskadi

que llevan aparte de llevar veinte años en deflación y tener un doscientos cuarenta por ciento de deuda con respecto al producto interior bruto llevan achuchando

yo creo que en euskadi no tenemos que cambiar el modelo tenemos un modelo que está funcionando tenemos tres astilleros potentes y en ese ecosistema naval sí nos gustaría sí sería

que allí donde estaba la naval siga habiendo actividad naval ya sea reparación o construcción de buques ahora bien bueno si existe una opción

viable que también pueda ser de futuro y también pueda ser de valor añadido yo creo que

no nos podemos negar por ley y en segundo lugar no nos tenemos que negar

por interés propio porque decía el señor casanova que no tenemos que dejar que las lágrimas no nos dejen ver las estrellas las inversiones son un poco como las estrellas como las estrellas fugaces uno las ve pasar durante un segundo y después desaparecen no podemos estar en ese esquema mental de bueno pues no si viene un inversor por ejemplo corrugados azpeitia si viene el inversor y quiere invertir equis millónes de euros en un momento dado en un lugar dado

a cincuenta kilómetros y en condiciones diferentes no no las inversiones son oportunidades que se ganan se aprovechan o se pierden y por tanto tenemos la opción en estos próximos meses de aprovechar la opción tenemos una opción viable hay que agradecer al grupo belga que haya apostado con no solo treinta y seis millónes de puja sino otros treinta de inversión adicional

que tenemos que sentirnos orgullosos de que haya grupos de este calado que quieran invertir en euskadi y en el futuro el gobierno ha de hacer lo que está haciendo discretamente sin que la ley le dé

discretamente poner en contacto a las empresas para que posibles fórmulas de aprovechamiento idóneo de esas tierras puedan llevarse a cabo

gracias señora presidenta buenos días de nuevo a todos la moción consecuencia de interpelación que nos ha traído hoy a esta cámara bildu sobre la futura utilización industrial del astillero la naval y sus terrenos es la historia de un fracaso que ya ha sucedido

en un error que tiene difícil solución con el actual entramado institucional es realmente dramático que esta situación se haya producido en un lugar como sestao en la comarca de la margen izquierda una zona de bizkaia en la que la precariedad laboral el desmantelamiento de la industria y del tejido productivo y las alarmantes tasas de paro sobre todo del juvenil

han sido traicionados por el gobierno nacional por el autonómico y por unos sindicatos que solo promueven políticas ideológicas financiadas con dinero público cumpliendo de esa manera con la agenda social globalista el cierre de la naval

pero también en los sindicatos de supuesta clase que han sido incapaces de contribuir a crear una economía al servicio de los trabajadores se han dedicado en cambio a poner a los trabajadores al servicio de los mecanismos y poderes financieros globales

basado en la especulación la deslocalización y la competencia desleal

nuestra economía cuántos planes de industrialización de regeneración económica de empleo se han anunciado y se siguen anunciando para la margen izquierda decenas cuál es el resultado global de que psoe y pnv se hayan dedicado a intervenir en la margen izquierda

señores de elkarrekin podemos se acuerdan de la visita que hizo en octubre del dos mil dieciocho su secretario general pablo iglesias a la naval recuerda que instó a los gobiernos de sánchez y de urkullu a rescatar la naval yo sí que lo recuerdo bien es cierto que

también cabe recordar que en febrero del año pasado también se paseó por sestao y planteó de nuevo la necesidad del rescate de la naval aprovechando la negociación de presupuestos qué sucedió

siento decirles que este gobierno de pnv psoe y el otro de psoe podemos han demostrado una falta de rigor absoluta

después de estar cuatro años en concurso de acreedores la naval no consiguió que ningún grupo asumiese su rescate ahora lo que quieren es instar a los propietarios al grupo logístico belga vgp a que hagan lo que ustedes todos ustedes

eguerdi on berriro bueno señor arruabarrena yo a las belgas no creo que haya que agradecerles la inversión

y darles la enhorabuena por la visión que han tenido y es una empresa que se dedica a adquirir buenos terrenos para darle usos logísticos y ser de otras empresas ha tenido buen ojo ha hecho una oferta para mí irrisoriamente baja pero ha sido la más alta y por tanto felicidades porque han hecho

lo único que voy a plantear es que seamos capaces de darle la vuelta a la situación y luego retomaré la cuestión

yo lo que le tenría que decir es que se puede no dominar un tema porque

lo que sí suele ser una receta un poco arriesgada es acompañar la ignorancia con la arrogancia

a rebatir o atacar los múltiples flancos abiertos que ha dejado en su intervención pero bueno le pido que repase un poco la actividad parlamentaria en los últimos años y quién ha hecho qué y así yo creo que tendría un poco más de ilustración sobre lo que estamos hablando y sobre lo que es el pelear por la defensa de la margen izquierda

si fuera la primera vez que sale el tema aquí quizá tuviera sentido situar la cuestión de la naval en el contexto global si nunca se hubiera hecho pero que llevamos bastante bastantes años haciendo bastantes años haciendo y hemos hablado

evidentemente ahí hay un trasfondo y hemos también introducido una reflexión sobre la situación general de la margen izquierda no es una reflexión sino propuestas concretas pero en un ámbito limitado

pero que tienen sus carriles y tienen sus cauces por los que ya se están tratando eskertzen diot arruabarrena jaunari

aipatzea creo que la cuestión de los proveedores también merecía ser puesta encima de la mesa porque hay

y cuando hablamos precisamente de que nos encontramos ante una situación traumática que se debería haber evitado yo he mencionado

los esfuerzos porque alguien puede pensar bueno pues si van a abrirse otras empresas no ha pasado nada

que se podía haber evitado yo creo

reabrir el capítulo de los agradecimientos porque si no luego no me va a dar tiempo

capaz de no levantar una muralla ante la propuesta inicial de eh bildu aunque tenía un contenido muy crítico directamente

buscar esos puntos de encuentro también ha tenido interlocutores en el gobierno que le han asesorado y que también han sido

como decía es un buen momento es un buen acuerdo y hemos conseguido prácticamente yo creo con este tema a estas alturas lo máximo que podíamos conseguir egia da gaiak

gaiaren konponbideari hemos tenido un problema serio como hemos dicho traumático pero es el momento del control de daños y no de los reproches de las responsabilidades

se pueden buscar sinergias que faciliten precisamente reconducir la situación

pues creo que hemos hecho un ejercicio eficaz de control de daños y hemos acordado

hay cabida para otras ideas y aportaciones al respecto de este tema pero tres cuestiones muy importantes y dos de ellas muy concretas que atañen al gobierno y que por tanto tienen que tener

una plasmación y una materialización en los tiempos en los que se han acordado por un lado el inventario de suelos que

a la hora de hacer una planificación de atracción de industrias cuando ni siquiera sabíamos

donde tenemos en güeñes un parque por ejemplo arangoiti creo que se llama donde la única actividad es un txikipark donde tenemos los mejores terrenos

reconvertidos en amazon o en costco que es otro supermercado o tenemos

el parque tecnológico en sí ha elegido una ubicación que creíamos que no era necesaria

felicidades yo les felicito sinceramente por este insólito acuerdo aunque he de reconocer que

me deja preocupado primero lamento que

ahora sí ahora hacemos un acuerdo y me preocupan esas felicitaciones porque no vaya a ser no vaya a pasar que este acuerdo

borrar los errores de una parte y para que la otra quede como que ha hecho algo útil

ha propuesto que se mantengan las grúas hombre no es un tema

es un tema de responsabilidad hablar de la margen izquierda no es tirar por elevación es que lo que pasa aquí

y vamos a votar no vamos a votar en contra ya le digo pero nos parece absolutamente insuficiente

es mucho más amplio que todo esto es decir hoy acabaremos aquí con este acuerdo ustedes efectivamente se felicitarán pero la margen izquierda seguirá fatal

y sí es verdad que ustedes han hecho llevan hablando del tema mucho tiempo

hablando del tema porque realmente la margen izquierda no ha notado para nada

que esos planes se han hecho pero en qué está mejorando la margen izquierda porque ese es el problema fundamental y es que repito

del problema es que hay que ver el tema en su complejidad creemos que

globalmente y más en serio pensamos que ahí hay mucha gente que está sufriendo y el plan de choque que se hizo anteriormente ya le digo no sé supongo

y por tanto lo que no quiero que parezca es que hacemos cosas como esos planes de choque

pero luego realmente los resultados no lleguen a la gente entonces lo que estamos proponiendo no es hacer otro plan de choque igual estamos proponiendo hacer algo de verdad

que de verdad funcione algo distinto y en esa línea van nuestras propuesta que hay muchas más y que tampoco queríamos hacer aquí un libro en vez de una enmienda que podemos sentarnos a pensar en ellas

de dejarnos un poco de postureo y de enfrentar el tema de la margen izquierda a fondo y en serio

mahaiburu andrea ahora resulta que los problemas de la naval vienen derivados por la culpa del entramado institucional que tenemos en este país con lo cual la solución es eliminar al gobierno vasco

mantener a los ayuntamientos quizá eligiendo al alcalde a dedo y como también los culpables son los sindicatos

como podrán comprender nosotros no compartimos en absoluto yo comparto con el señor casanova que

es un buen acuerdo porque demuestra el compromiso de cuatro grupos parlamentarios que representan una inmensa mayoría de este parlamento y que pone de manifiesto la voluntad para poder avanzar sin caer en reproches evidentemente siempre tiene que haber y mucho más en un debate parlamentario margen a la crítica

reproches creo que se ha hecho un buen recorrido y que cada cual en la parcela que le correspondía ha sido generoso con el otro para intentar conseguir me felicito por ello porque creo que este acuerdo repito y reitero tiene

de lo que algunos en un principio pueden presuponer por qué porque sientan bases en diversas cuestiones que creo que son fundamentales y una de ellas es nuclear y que es el poder sentar las bases precisamente para construir una planificación

de las comarcas que hemos mencionado y sobre todo porque inciden en la apuesta de este gobierno y también de los grupos de la oposición que han firmado la transaccional en el futuro

en definitiva creo que se trata de cuestiones claves para el desarrollo futuro de esas comarcas por tanto este acuerdo considero que tiene un calado y una trascendencia muy muy importantes el señor gil vegas decía que este acuerdo era insuficiente

cierta concreción yo no le voy a negar evidentemente si hacemos un análisis somero de las necesidades de las dificultades de las carencias también de las virtudes que puedan tener estas comarcas y especialmente la margen izquierda podemos compartir que evidentemente esto puede ser insuficiente pero estábamos hablando

concreta a la que nos hemos ceñido para eso para abordar cuestiones que van más allá de lo que es la cuestión concreta de la naval precisamente se celebró

considera que también es insuficiente y yo no comparto su visión catastrofista

que va a seguir dando resultados y desde luego si hay margen de mejora

para mejorar los resultados y para intentar desde luego renovar también no solo nuestro compromiso sino también renovar la estrategia de cara

a aquellas variaciones en el diagnóstico que pudieran darse a través de los cambios que se producen a través del tiempo pero yo ni comparto su catastrofismo ni su fatalismo que además considero

partido socialista de euskadi partido nacionalista vasco tiene un compromiso expreso

que conforman euskadi y desde luego no solo a través de políticas concretas sino también a través de políticas transversales construir un país y desde luego atender
de alguna manera no solo a las demandas sino a los problemas que tiene nuestra ciudadanía eskerrik asko eskerrik asko andueza jauna

el señor soto no ha bajado pero bueno como antes ha dedicado toda su intervención a la crítica

que le quería hacer y es que lo cierto es

en el sector naval nos hemos dado un modelo y en ese modelo tenemos astilleros públicos sobre todo del sector militar todos entendemos por qué se hace eso y

en el sector de barcos mercantes y es lógico y es un sistema que no funciona mal tenemos dos nichos principales donde funciona muy bien y es precisamente donde más valor añadido se genera y es en los cruceros y en la pesca el astillero mayor del mundo de cruceros es

italo francesa y los principales astilleros de buques pesqueros están en europa no hay que ir hacia modelos desarrollistas de bajo coste laboral y copiarles sino que hay que desarrollar el modelo que tenemos nosotros en europa y si en ese modelo hay

intentemos aprovecharlas siempre entendiendo vuelvo a decir que el margen que la ley no da ningún margen y por tanto

intentar facilitar poner en contacto a gente en fin cositas que todos los gobiernos hacen y que también en este caso seguro que harán señor gil me encanta ver

de la política y en esa actitud tan antiliberal de comprar

creía que lo hacían como excepción en casos como bankia donde los acreedores no eran cuatrocientos cuatro

de ciudadanos en todo caso y termino reincidir en que en ese espacio tan adecuado para la reconstrucción o reparación de buques bueno pues sería ideal que hubiese reparación o construcción de buques pero si se abren otras oportunidades que

acordes al plan general de ordenación urbana de sestao y que

yo creo que no son opciones peores no son opciones menores y por tanto tenemos que saludarlas y ponerlas en valor

señorías miembros del gobierno señor lehendakari que nos acompaña es ya el último punto del orden del día ha sido un pleno hoy muy intenso intentaré ser breve y centrarme en la cuestión fundamental

propuesta a esta cámara relativa a la reducción del tipo impositivo aplicable a los servicios de peluquería

y económica nosotros consideramos importante que este sector el sector

de tipo estético pues ha sido también uno de los sectores que entre todos

llevado a cabo algunas otras actuaciones para ayudarles más yo creo que es importante ayudar y reconocer a este sector también para visibilizarlo y una de las medidas que consideramos que puede ser razonable es proponer porque aquí en este caso lo que se pide al parlamento es que el gobierno

y que en la media de lo posible pues lleve a cabo una bajada para este tipo de servicios

este papel por tres tipos de razones señorías en primer lugar por una razón de equidad en segundo lugar por razones de tipo económico y en tercer lugar si me permiten por un factor social humano y de visibilización también

los servicios de peluquería al ser considerados un servicio esencial

ciertas ayudas a las que no han podido tener acceso por diversas razones

de trabajo pero eso no ha implicado el cierre pero claro han tenido que reducir muchísimo su actividad

por otra parte por otra parte desde un punto de vista económico

que han reducido también la carga de trabajo que han tenido las peluquerías miren no solamente el factor sanitario que es importante porque claro cuando estamos en esta situación

ahora de crisis y pandemia crisis sanitaria que vemos reducida

una mayor movilidad o que en el fondo que evitan o que modulan nuestro consumo entonces aquí hay un pequeño factor también psicológico que en tiempos de crisis esto más o menos está

en temas económicos en tiempos de crisis es habitual que el consumidor

pues que rebaje el consumo y una de las cosas en las que suele recortar pues pueden ser este tipo de servicios hay otro tipo de factor económico que se refiere también pues lógicamente personas que desgraciadamente

o han visto muy reducido también su capacidad de generar ingresos pues evidentemente

y luego evidentemente el factor sanitario que no se nos olvide claro también reducimos la movilidad y también las personas pues aunque podamos realizar ciertos desplazamientos y demás para acudir a estos centros

cierto tipo de salidas y una de las salidas que parece que está también demostrado que se han reducido

o este tipo de desplazamientos o movimientos para llegar a estos locales donde nos presten este tipo de servicios todo ello

la situación también que ha afectado a muchísimas personas que desgraciadamente han perdido su empleo y están en una situación económica

y el tercer factor hemos dicho el factor de equidad digamos un factor de compensar de alguna manera el segundo factor era el factor más netamente económico y el tercer factor que me gustaría señorías

y esa necesidad también yo creo de visibilización nosotros en este parlamento presentamos los grupos distintas iniciativas para reconocer a ciertos grupos instituciones sectores del trabajo etcétera y yo creo que también ha llegado la hora que reconozcamos

pequeños servicios relacionados con la estética yo creo que es necesario hoy reconocerlo en primer lugar

autónomos muchas muchísimas también son mujeres y hombre todos sabemos evidentemente que todavía hay mucho trabajo pendiente en temas de conciliación en temas de igualdad etcétera

las mujeres que las tienen en nuestra sociedad en ciertos aspectos sociales no voy a entrar en este debate pero vamos

y todos tienen algo de psicólogos todos tienen algo de psicólogos las peluquerías señorías ustedes lo saben lo sabemos todos son lugares de encuentro en tiempos digamos no quiero decir de normalidad porque ya normalidad no sé lo que va a ser pero saben todos ustedes señorías que las peluquerías son sitios más o menos de encuentro son lugares donde

que es en ciertos momentos sobre todo desconectar son lugares

nos escuchan nos hacen caso o a veces parece que nos hacen caso y esto claro eleva mucho o no suben también la autoestima yo creo que esto es importante este factor humano esa

en estos tiempos de pandemia donde lo cierto es que las medidas de contención necesarias todo tipo de las restricciones que se establecen para contener la expansión

de lo que muchos de nosotros queremos reconocer y este tipo de viajes de desplazamientos que se hacían antes naturalmente a centros de peluquería

más limitados evidentemente por eso

presentar hoy esta iniciativa agradezco mucho la buena disposición de los grupos parlamentarios que sostienen al gobierno con los que hemos llegado a un acuerdo

tanto los grupos del gobierno como evidentemente nosotros para llegar a un punto de encuentro a nosotros

tanto debato y discrepamos en muchos puntos pero en este punto pues mire hemos sido capaces de llegar un acuerdo igual que con la señora pérez ezquerra del grupo socialista

una reducción concreta al diez por ciento pero bueno entendemos que este acuerdo es positivo y que sobre todo es un paso en la buena dirección y ya señorías para finalizar

para esta iniciativa en la que solamente se propone una cosa que es bajar las cargas fiscales bajar las cargas

golpeado por la crisis que realiza una labor económica importante que tiene dificultades para mantener sus negocios y que también realiza una labor social

gracias presidenta no es la primera

y es que efectivamente es un tema que viene ya de años atrás

en el caso concreto a las peluquerías ocasionó un perjuicio grave puesto que supuso a subir el tipo reducido del ocho por ciento

una subida de trece puntos porcentuales lo que supuso un duro golpe para un sector compuesto por pequeños negocios que desencadenó en cierre de muchos establecimientos al no poder trasladar esa subida a los precios finales o al asumir la misma entraron unas pérdidas

precisamente por ello desde el partido socialista ya en su momento instamos al gobierno de rajoy a reconsiderar la medida y volver a situar el sector de la peluquería en un

y presentamos otra en el dos mil diecisiete seguimos defendiendo la misma postura

el aumento de la progresividad del sistema fiscal consideramos que el sector de la peluquería tiene una relevancia económica y social muy importante en nuestro país

en su gran mayoría que mantienen todavía hoy un número importante de empleos

es de los pocos sectores que están regentados por mujeres casi en su totalidad y están jugando un papel esencial y de sostenimiento de la dignidad de la persona

ahora además nos encontramos en una situación muy excepcional con muchos sectores económicos afectados

incluso dentro de un mismo sector no se registra la misma evolución en función del territorio o comunidad autónoma en el que se encuentre la pandemia está afectando de forma

superado lo más crudo de la crisis se tendría que haber vuelto a instaurar el tipo del iva reducido del diez por ciento tal como prometió

entendiendo que se trataba de una medida coyuntural pero ahora ante una revisión y reforma fiscal por parte del gobierno central y dada

debe verse dentro de una reforma integral de este impuesto que debe analizarse qué sectores están más afectados para ver cuáles se pueden reducir pero tocar

y no es la forma de abordarlo asimismo lo piensan ustedes ciudadanos en el congreso

y estará abierto no solo a las universidades y a las empresas que se dedican al ámbito financiero sino también a los técnicos tributarios de las comunidades y entidades locales y a cualquiera que quiera plantear cualquier idea o documento en este sentido

se van a revisar todos los tipos y si bien españa hace un mayor uso de los tipos reducidos que otros países de europa el gobierno central se ha comprometido a analizar este impuesto con calma de ahí la enmienda transaccional a la que hemos llegado donde

dentro de esa revisión integral del impuesto y acorde a la normativa europea y entre otros sectores precisamente

y mientras tanto es fundamental seguir aprobando medidas de apoyo para pymes y autónomas que se están viendo más afectados por la pandemia y medidas de contención de la misma como son los erte la prestación económica de cese aplazamiento de impuestos avales ico

moratorias en el pago de alquileres o la posibilidad de pasar temporalmente al régimen de estimación directa para adecuar los impuestos a la reducción de la actividad para terminar agradecer el esfuerzo por llegar a esta enmienda transaccional y la actitud del grupo proponente especialmente en estos momentos de pandemia ya que este tipo de acuerdos
desde luego facilitan la convivencia y contribuyen a no crear más tensión muchas gracias eskerrik asko

la iniciativa que hoy debatimos pretende aliviar la situación de un sector el de las peluquerías afectado por la crisis de la covid

pero antes de defender nuestro texto me gustaría hacer un par de puntualizaciones porque señor gordillo aunque hayamos debatido hoy debatiremos en un buen tono sí que me ha sorprendido que hoy

dejar de comentarle un par de cuestiones siempre desde el respeto y desde el cariño primero dice el grupo popular ciudadanos en su iniciativa en la motivación de su iniciativa que el sector cuenta con una tributación por el impuesto y lo leo así por el impuesto sobre el valor añadido que solo pone trabas

estoy de acuerdo esta rebaja supondrá un alivio estamos de acuerdo

quién fue el artífice de la subida del actual tipo impositivo el gobierno de mariano rajoy el gobierno del partido popular

de manera temporal pero nunca lo corrigieron y tuvieron ocasiones para hacerlo

luego me referiré pero ya es casualidad que el partido popular tuviera la oportunidad de reducir el tipo impositivo cuando estaban en el gobierno

segundo traen un debate a esta cámara que no es competente cuando hace unas semanas

lo llevaron ya al congreso y al senado y además con un resultado positivo

lo que me suscita la pregunta de qué interés particular tienen en abordar aquí este debate que ya se ha sustanciado donde corresponde donde está la competencia aquí no tenemos por desgracia capacidad para regular el iva

propuesta por ustedes entonces para qué debatimos hoy este tema

ni tampoco que deba ser una rebaja circunscrita a este colectivo los damnificados han sido muchos y

me gustaría remarcar en todo caso nuestro apoyo a la reducción del iva al sector de las peluquerías estéticas

que ya manifestamos cuando se debatió como antes he dicho esta misma propuesta en el congreso de los diputados el pasado veintitrés de marzo y también en el senado un par de días después si bien nuestro grupo lo hizo defendiendo la necesidad de una reforma integral y eso es lo que venimos a hacer hoy aquí dimos nuestro sí convencidos en madrid

al sistema fiscal para adecuarse a las transformaciones sociales y económicas un sistema fiscal

así que si queremos ser más efectivos responsables y no repetitivos vayamos a dar un pasito más adelante

una reforma fiscal general de este impuesto y este es precisamente

y qué más nos ha llevado a presentar un texto alternativo para

y consecuente transaccional primero porque creemos que la iniciativa original quedó desfasada en tanto que

la cual salió adelante y contó con nuestro apoyo de hecho fíjese incluso que pensé que retirarían o dejarían la iniciativa vamos a decir

la dejarían morir en el listado de iniciativas el segundo motivo es que el grupo vasco popular ciudadanos

y no a otros servicios vinculados al sector como los servicios de estética y barbería y la iniciativa que nosotros apoyamos en el congreso sí que engloba todos esos y

proponen en la iniciativa parece que no engloba todos los servicios vinculados al sector de la peluquería

matizarlo y dejarlo claro en la transaccional propuesta competencias

les digo que no tengo ni tendría ningún problema en debatir este tema en este parlamento con el grupo popular y con el resto de grupos políticos si grupos como el suyo en madrid trabajasen por un mayor autogobierno de euskadi dependiera de este parlamento y de las diputaciones forales

le animo a que pelee señor gordillo en madrid la modificación del concierto económico para concertar todos los impuestos los nuevos incluidos que alguno queda pendiente

dejaremos de instar al gobierno de españa que modifique cualquier cuestión en materia tributaria hala ere

señor gordillo con lo que es usted si le viera le veo poco original he hecho un repaso a las iniciativas en materia de iva presentadas en el congreso durante el año anterior

y observo que no hacen más que presentar en este parlamento las mismas iniciativas debatidas en madrid con lo que en breve asumo

la de los espectáculos culturales pirotécnicos la de los servicios funerarios o la del sector turístico

el diario de sesiones del año pasado todos ellos sectores muy relevantes y además muy castigados por la crisis pero no perdamos el tiempo con asuntos ya discutidos y debatidos

donde toca porque a estas alturas del debate lo único que a mí me da la sensación

y con debates repetitivos y con mensajes de bajadas de iva por aquí por ahí

no consiguen ayudar al sector porque eso ya se ha conseguido en el congreso que es donde tienen la competencia sino

tan relevante para sostener un buen sistema de servicios públicos y nuestro estado de bienestar me da que va esto contra una pedagogía tributaria

se está realizando un esfuerzo muy importante por las diputaciones y por el gobierno con programas de formación y sensibilización con acciones educativas orientadas a elevar la conciencia fiscal

como acción ética y ciudadana y creo que tenemos que ir por esa vía visión que asumo compartirá conmigo

que será así eh señor gordillo y por último y es verdad que una bajada de iva no es una solución definitiva y creo que algunos

y creo que tiene razón no es la piedra filosofal hay otro tipo de medidas que hay que tomar en el sector un sector que como décimos está

y muy feminizado y ello debería implicar otro tipo de medidas

a las medidas tributarias que asumido y compartido con usted

pero con nuestra enmienda y en particular con la transaccional pretendemos ampliar el impacto a más sectores y servicios incluido el sector de la

quería agradecer al grupo popular ciudadanos al señor gordillo

quería agradecer que haya valorado nuestra visión más global de análisis global en materia

y también agradecer a aquellos grupos que vayan a apoyar nuestra transaccional beste barik eskerrik asko

buenos días otra vez a todos y a todas decir que

votaremos a favor de la transacción pero sí que es cierto que le tengo que hacer algunas puntualizaciones

y varios comentarios algunos de ellos ya se los han trasladado pero en cualquier caso

voy a darles tal vez algún otro sentido la verdad es que desde nuestro grupo estamos de acuerdo en quitarle protagonismo a los impuestos indirectos siempre y cuando esta reducción se aplique posteriormente

que en ocasiones no pasa en cualquier caso sí decirle que nos sorprende que el partido popular ciudadanos

parlamentario partido popular ciudadanos que por lo general siempre ha tenido una actitud tendente a apostar por los impuestos

y no desde luego por lo que sí resulta más progresivo los impuestos directos en este caso plantee reducciones y además lo haga como

escalonada en el congreso de los diputados parece ser también como bien se decía pues con un alarde de acercamiento a ciertos sectores muy concretos en fin más en términos creo partidistas y electoralistas que

al bien de dichos colectivos o sectores en fin creemos que es bastante cínico que quien forma parte de un grupo parlamentario que en dos mil doce practicó

a plantearnos eso mismo que tenemos que reducir

y además es que la política fiscal que el señor rajoy planteó en su mandato fue absolutamente regresiva es decir que hubo

subidas impositivas del iva prácticamente en infinidad de productos

benefició como suele ser la política habitual del partido popular en este sentido benefició a las rentas más altas y a los grandes patrimonios

de esta formación y entiendo también a su vez de ciudadanos

a que ahora el gobierno de españa en este caso

que la realidad de la política fiscal y la estructuración en este sentido de los ingresos afecta después

crítico de pandemia y la verdad es que en su momento la política fiscal del señor rajoy contribuyó a que ahora mismo tengamos un estado del bienestar

que tiene que hacer frente a un momento de pandemia siendo y además debería ofrecer datos siendo según el eurostat datos correspondientes es verdad que con

correspondientes al año dos mil diecinueve dice así nuestro país se encuentra en la décimonovena posición en relación a los ingresos procedentes de los impuestos y contribuciones sociales con el treinta y cinco coma cuatro por ciento del pib situándose muy por debajo de la media europea cuarenta y uno coma uno por ciento del pib y la media de la zona euro cuarenta coma dos por ciento del pib francia y dinamarca nos superan por mucho

cuarenta y seis por ciento la segunda en fin que desde luego la idea que no tiene que subyacer a esto es que tienen que aplicarse rebajas fiscales y que los impuestos son malos básicamente que esa es la pedagogía que por lo general ustedes tratan de aplicar

de esta cuestión en concreto en términos más generales y más doctrinales sino que para poder mantener el bienestar comunitario y un escudo social como

decir es necesario disponer de una estructura fiscal que permita que eso sea posible en cualquier caso en relación con esto ya le digo vamos a apoyarlo porque concretamente

y refiriéndonos a la cuestión del iva y además en la transaccional también se hace una mención

al sector de las peluquerías sí que consideramos que en algún momento tendrá que volverse al tipo

se aplicaba y bueno en este sentido creemos que es acertada la iniciativa aunque y tampoco quiero reiterarme demasiado desde luego este no es el lugar

creemos que debiese ser además que ustedes son tan garantes de la soberanía nacional entendiéndola como la defensa a ultranza del centralismo en términos competenciales creemos que traer aquí una cuestión que de poco va a servir es decir más de fuego de artificio

va a conllevar que haya un acuerdo general de todos los grupos parlamentarios

y en cualquier caso la iniciativa es positiva

toca que ya sabe usted dónde es luego realmente se aplique cuando corresponda como le decía la señora pérez y no tengo mucho más que decirle más allá de invitarle a que si en alguna ocasión quiere tener un debate en relación con

en euskadi y también quiera incluir ahí lo que tiene que ver con la capacidad de autogobierno en este sentido lo haga pero ya en términos más generales

de lo que tiene que ver con sectores muy concretos y además teniendo presente que todos y todas conocemos lo que ya se ha producido en términos de reflexiones de aportaciones

las mismas posturas pues no sé muy bien para qué en cualquier caso ya le digo apoyaremos la iniciativa

amnistia fiskala onartzen zuen bitartean paradojas de la vida diría uno

ba aldatu zituzten tasa gutxitutik tasa orokorrera

y sobre todo con el sobredimensionamiento que se le ha dado voluntariamente

a este impuesto y a la recaudación en general de los impuestos indirectos en detrimento de los impuestos directos dejando así de lado de una manera más que evidente la opción a hacer una tributación más justa y más progresiva que dan estos últimos no podemos dejar de reclamar hoy en este atril pues la competencia sobre el iva y se lo digo

para las haciendas vascas por qué no por qué no decidir aquí los tipos del iva y no ser unos meros recaudadores de impuestos

temas como tener que andar reclamando hoy a madrid lo que vamos a tener que reclamar

y esa es una reclamación que hemos hecho desde eh bildu y seguiremos haciendo en esta casa

las casas en las que tenemos voz y palabra porque insistimos en que tener todas las herramientas es nuestra mejor manera de hacer realidad el país que queremos porque es la manera en la que podemos decidir entre todos y todas qué país queremos construir y como decía y las personas que me han precedido lo han comentado también este tema

con la crisis de la pandemia este tema viene de atrás de muy atrás concretamente de la última gran crisis anterior desde el año dos mil ocho

de las que habíamos tenido y eso es concreto en dos cuestiones muy básicas que implican a este sector por una parte menor frecuencia de la visita

dos mil ocho pues se encargó de agudizar el partido popular en el dos mil doce

en una subida auspiciada por un partido popular que modificó

el estatus fiscal de este sector de pasar de primera necesidad y entonces los cambió

entre otras muchas barrabasadas que hizo en ámbitos fiscales y los otros prefiero no mencionarlos y siendo esto así por eso decía que esto es

ya el sector decía que había más de ocho mil ochocientos negocios cerrados

de la crisis del coronavirus beraz krisi handitik datorren egoera larria

aldatu izan da azken urteetan por lo tanto esto no es un tema fruto de la crisis del coronavirus insisto porque no hay duda que esta crisis aunque sí es verdad que esta crisis ha tenido y está teniendo un grave efecto en el sector empeorando una situación que ya venía lastrada

que como se ha comentado fue considerado esencial al inicio de la pandemia

en vigor un sector que sin duda alguna también ha sufrido merma de clientes por la propia pandemia y por la situación social que se ha generado por la limitación de la movilidad entre otras

con una fuerte presencia de autónomos y negocios de pocas trabajadoras como bien se ha dicho y digo trabajadoras porque como se ha comentado es un sector fuertemente feminizado

apenas tienen los cuarenta y cinco años por lo tanto una vez más son las mujeres jóvenes las que vienen a sufrir las consecuencias de la crisis que venimos ya arrastrando

en este ámbito de la economía beraz sektoreak berak eskatzen

que decir que me ha sorprendido esta transaccional nosotras también vamos a hacer un voto a favor de la transaccional

que haga lo que debería de hacer pero insisto

y eso lo vamos a seguir poniendo encima de la mesa en este parlamento

pero de verdad que me resulta curiosísimo ver a un representante de ciudadanos en el parlamento vasco

cuando tocaba en madrid a mí me sorprende sinceramente me sorprende

que traiga este debate cuando sabía perfectamente cuál era el posicionamiento de todos los grupos a mí no me importa debatir debatiremos todas las veces que haga falta pero sí que creo que

pero sí que la suya su propuesta tenía unos matices respecto a la propuesta del partido popular presentada en el congreso de los diputados tenía el matiz que su grupo allí

pero resulta que en madrid el partido popular votó en contra de la propuesta de ciudadanos y aquí el partido popular ciudadanos nos presenta una propuesta similar a la del pp

de la pandemia vamos a decir bueno esas son sus cosas sus cuestiones

y lo que luego presentan aquí nosotros tenemos claro que vamos a seguir defendiendo

a todos los grupos por este debate han surgido cuestiones que la verdad que yo creo que merecerían casi un debate monográfico que

para reivindicar este sector para reivindicar particularmente también y visibilizar este sector el sector de la peluquería y también los servicios de estética

que a pesar de las diferencias pues finalmente se vote a favor de esta iniciativa muchas gracias presidenta eskerrik asko gordillo jauna norbaitek hitza hartu nahi du